euskal ekonomia hazten da insistía usted consejero mucho en esa idea que haciendo un análisis comparativo de los datos

economía vasca que aunque hubiera una desaceleración eso era un crecimiento menor pero un crecimiento insistía usted quiero detenerme

vasca crece crece como para poder generar empleo decía usted y además un crecimiento fuerte desde nuestro grupo parlamentario siempre solemos

cuál es el perfil del político que la sociedad vasca demanda pide y creemos que una de las características importantes es ser

responder con calma y con corrección a pesar de que las situaciones que uno pueda tener delante no siempre sean las más favorables o las que más le gusten a uno las más cómodas para una persona pero sí responder con actitud positiva ante situaciones que tal vez no sean las mejores pero la sociedad vasca pide eso rigor en el análisis de los datos

la realidad calma corrección respeto y

que ponga el énfasis en este dato en que la economía vasca crece no obstante siendo así y con los datos que usted tiene nos gustaría saber cuál es la previsión que hace de cara a la evolución de la economía vasca en el futuro hortik gure galdera zorroztasunez

de forma rotunda euskadi cuenta con una situación económica sólida potente y que nos va a permitir durante un tiempo ser optimistas

se revisó del dos coma tres al dos coma dos por ciento para este año diecinueve esto significa que nos movemos en valores de crecimiento sólidos

izango direla uste da esta revisión de una décima se enmarca en un contexto de desaceleración de las economías de nuestro entorno cabe observar las previsiones para el diecinueve realizadas por ejemplo por alemania

a la debilidad de sus socios comerciales francia por ejemplo del uno coma seis al uno coma tres la tensión provocada de las crisis de los chalecos amarillos no es ajena a esta cuestión

por tensiones políticas y una demanda bastante apática reino unido del uno coma cinco al uno coma tres ahí están las cuestiones como el tema del brexit

en nuestro caso la industria es la que ha estado experimentando un relativo descenso de la actividad

fundamentalmente por el sector de la automoción lo que nos sucede es que al ser un país pequeño cualquier impacto sectorial puntual nos afecta de una manera considerable pero en términos de promedio anual la variación del sector industrial se situará

dos mil veinte por lo tanto un crecimiento también a considerar

su intensidad si bien será el sector más dinámico mientras que los servicios marcarán un perfil de crecimiento más estable y sostenido

se cifra para este año dos mil diecinueve en el uno coma cinco por ciento y para el año dos mil veinte estimamos un aumento del uno coma tres por ciento y estas cifras implican

este año y doce mil quinientos empleos más el año que viene

y se situará en niveles inferiores al diez por ciento en ambos años con lo que vamos a cumplir nuestro objetivo de legislatura es decir este crecimiento económico va a permitir crear empleo y que la recaudación que nos permita financiar nuestras políticas públicas efectivamente existe una desaceleración pero invito a que no nos obsesionemos porque nuestra económica va a seguir funcionando y creciendo en sus valores potenciales ya en el conjunto del dos mil veinte el avance económico se situará según nuestras previsiones en el dos por ciento por lo tanto

y se está generando empleo hori guztia kontuan izanda eusko jaurlaritzaren

y de su partido incluso en esta cámara ante un conflicto laboral

por parte de los sindicatos que convocan una huelga de estar secuestrando a sectores de la ciudadanía que no es bueno para la imagen del país

le escuchamos hace unos años encararse con un grupo de sindicalistas y espetarles a la cara aquella famosa frase de es este

de los trabajadores y trabajadoras condiciones que se han deteriorado de forma grave

del mercado laboral con un trabajo parcial un tercio con un trabajo temporal un tres por ciento de media de pérdida de poder adquisitivo de los salarios y unos jóvenes que tienen el salario medio de mil euros que son

que su gobierno vende como un éxito pero es una de las tasas de paro más altas del mundo no solo entre las economías desarrolladas sino entre el conjunto de las economías a ustedes les decíamos la semana pasada que tienen una fórmula con la que resuelven todos los problemas primero dicen que están preocupados y luego confían en que se llegue a una solución

del mercado laboral y confiamos en la voluntad de las partes para arreglarlo mediante la negociación colectiva pero les voy a decir un secreto una de las partes

y la patronal no tiene voluntad de arreglar esta situación porque es la patronal la que se está beneficiando con preocupación y confianza tampoco este problema lo van a resolver el problema de la desestructuración del mercado laboral y el problema de la pérdida de derechos sociales salariales

es un problema estructural que necesita un plan decidido de acción un plan proactivo necesita un plan

que se ha creado para que pase lo que está pasando en beneficio de la patronal y necesita un plan de reconstrucción de esos recortes y un plan de reconstrucción de derechos lo que le pasa es que ni hace ni deja hacer cuando son los sindicatos los que están consiguiendo mejoras mediante la lucha mediante la huelga mediante la movilización y son estos sindicatos los que están

en el mundo laboral su gobierno se significa por una crítica sistemática hacia el mundo sindical

las cláusulas sociales o la ley contra la deslocalización de empresas ustedes también se posicionan en contra a usted le pasa que ni hacen ni dejan hacer

la semana anterior una pinza una pinza conservadora pero una pinza en la que hay dos partes como en cualquier pinza dos partes de madera que son las derechas que representan el pnv

el partido socialista de euskadi en esa pinza conservadora sin el partido socialista de euskadi tampoco se podría poner freno a la lucha por los derechos y a la recuperación de derechos de los trabajadores dejen esa pinza póngase al lado de los derechos de la mayoría de este país

a reconstruir derechos y dejen de ser una pinza una pinza de freno para los derechos para los salarios
y para la mejora del mercado laboral eskerrik asko casanova jauna lehendakari jauna zurea da hitza

en relación a las condiciones de vida de los vascos y de las vascas para llevarlo a su terreno un terreno que es recurrente en las intervenciones

es recurrente en el sentido apocalíptico que ustedes quieren reflejar de lo que es la situación que de manera contrapuesta es la real

y por lo que los propios datos reflejan incluso en el ámbito de lo que son las relaciones laborales con más del sesenta y cuatro por ciento de las empresas con convenio colectivo usted ha hecho referencia aquí a lo qué es gobierno a lo qué es patronal ahora ya la pinza con los partidos políticos mire yo le voy a decir lo que es el

del gobierno vasco el objetivo del gobierno vasco es garantizar unas condiciones de vida dignas a todas las personas y está relacionado con la prioridad social por ejemplo de los presupuestos en euskadi en el año dos mil trece dedicamos seis mil trescientos millónes a gasto social

el sesenta y dos por ciento del gasto presupuestario era social y este año será el sesenta y siete por ciento señor casanova el país de nuestro entorno que más invierte y mejor asistencia sanitaria ofrece que más ayuda a quien más lo necesita con la renta de garantía de ingresos que hay más ayudas de acceso a la vivienda que crecen las becas educativas y la formación dual invertimos más en zonas desfavorecidas

ofrecemos más ofertas públicas de empleo y crecen las ayudas a las familias y conciliación le diré también que somos el país de nuestro entorno

mayor renta disponible para las familias menor tasa de pobreza y mayor inversión en gasto social señor casanova este esfuerzo colectivo sin embargo

sin embargo este miércoles ustedes han sido los primeros en aprobar los seis decretos ley que el gobierno español ha presentado en el parlamento

allí sí aquí no apoyar al gobierno español sí apoyar al gobierno vasco no nadie lo entiende señor casanova beraz zuen jarrera ulergaitza

la estabilidad política de euskadi y se confirma la desaceleración en la economía vasca dada la situación política y económica de euskadi qué es

señor lehendakari evidentemente también existen otras cuestiones de los que preocuparse

ya hemos visto el debate que se ha dado estas semanas sobre la situación de la economía vasca y las palabras del señor azpiazu que a pesar de haber bajado las precisiones plantea el optimismo

de propaganda sin embargo más allá de la aparente buena situación de euskadi creemos que esos datos no pueden leerse desconectados ni del contexto económico mundial

para la económica global el propio consejero acaba de decir acaba de reconocer

la amenaza de una guerra comercial que puede afectar a sectores muy importantes para nosotros como el acero

o una nueva crisis está ahí y sería irresponsable como gobierno no prever estos escenarios

de dos velocidades a la que ustedes nos están llevando esta situación es el pan de cada día de muchas familias

de darles una respuesta ahora que no hay que preocuparse por la economía o que no había que preocuparse

por la incertidumbre y las turbulencias internacionales con un tejido productivo con mucha menos industria que en dos mil ocho se sigue

euskadi está mucho menos preparada para aguantar una posible crisis este dato debería ser suficiente para que el gobierno se plantee como una prioridad poner medios para que no se repitan los dramas sociales que vivimos en dos mil ocho

por mejorar nuestro sistema de protección social por ejemplo y no con esa propuesta de ley de garantías de ingresos que han hecho pero también por apostar por una transición ecológica de la economía que nos permita consolidar sectores y empleos de futuro y frene

eta entzun akordioak lortzeko benetako borondatearekin en una situación de inestabilidad política en el estado y de incertidumbre económica mundial nos preocupa seriamente que el lehendakari que tiene que hacer que euskadi esté preparada para no dejar a nadie atrás

no tenga capacidad negociadora suficiente para pactar con la oposición las medidas necesarias para protegernos lehendakari de verdad espero que la ciudadanía vasca no pague

señor martínez seguiré encantado y seguiremos encantados de que

a compararse en lo que es la evolución de la cohesión social y a valorar la cohesión social de la comunidad autónoma de euskadi como la mejor

en todo caso mi preocupación es que el eje básico de actuación de todo el gobierno sea la generación de oportunidades de empleo de mayor calidad habla usted de desaceleración de la economía

hemos reducido una décima la previsión de crecimiento y el crecimiento medio para la zona euro estará este año en torno

y en euskadi será del dos coma dos por ciento el doble por lo tanto desaceleración en el contexto general sí pero también la realidad que nos afecta a nosotros diferente en relación a lo que pueda ser la situación que afecte a la media del conjunto de la unión europea la evolución de la economía vasca es positiva cinco años creciendo este año y el siguiente se mantiene la previsión de crecer más del dos por ciento y este crecimiento genera empleo y adelantamos como se ha dicho ya un año el objetivo principal del gobierno y del país el paro por debajo del diez por ciento en una comunidad

en este momento del veinticuatro coma tres por ciento en el sentido del conjunto de la economía ocho puntos de diferencia con respecto a lo que es el peso de la industria en la media del conjunto del estado español

avanzando para alcanzar los objetivos de la legislatura los objetivos del programa de gobierno del gobierno de coalición partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi incentivar la creación de cincuenta y ocho mil empleos primera oportunidad laboral a veinte mil jóvenes

proyectos de expansión o innovación y esto se consigue señor martínez actuando sobre tres pilares empleo como prioridad

público privada como estrategia y confianza y estabilidad institucional como marco para que la economía productiva real siga invirtiendo exportando e innovando este ecosistema es el que crea oportunidades y llevamos seis años consecutivos ganando empleo a empleo

en relación a lo que es otro tipo de economía productiva de otras comunidades autónomas

afiliadas a la seguridad social que en marzo del año dos mil trece y también ustedes tanto que apelan al diálogo también ustedes pueden contribuir a tomar decisiones favorecedoras del crecimiento y el empleo lanbide formación dual política industrial innovación

apertura al exterior emprendimiento relevo generacional en los servicios públicos directrices presupuestarias

es la acción del propio gobierno ustedes pueden sentarse con el gobierno vasco y pueden contribuir a mejorar el crecimiento y la calidad de empleo en todo caso euskadi avanza eskerrik asko

sí gracias presidenta este año dos mil diecinueve se conmemora el centenario de la creación de la organización internacional del trabajo

europa la primera guerra mundial indujeron a los países que se habían enfrentado en ella a buscar instrumentos que supusieran que la sociedad

sin el recurso a la guerra que tantos daños había causado así en el contexto de los pactos que pusieron fin a esta guerra en el pacto de versalles se crea la sociedad de naciones y como organismo adherido a ella la oit

día en que en sesión plenaria de la conferencia de paz se adoptó el acuerdo de creación de la oit y el veintiocho de junio día en

incorporada a la firma del tratado de versalles la oit se crea con la intención de que el mundo transitara por un camino en que la justicia social

y entre los distintos agentes dentro de cada una de ellas es ciertamente un organismo

si bien la sociedad de naciones tuvo que ser desmantelada ante su incapacidad para afrontar los problemas surgidos entre países se ha mantenido en el tiempo y hoy es el organismo especializado más veterano de los que están adheridos a las naciones unidas la constitución de la oit

su carácter tripartito con participación de la administración y de los representantes de los trabajadores y empresarios fue una de las novedades de su creación y hoy sigue siendo una seña de identidad relevante del organismo internacional

estados miembros se han volcado en festejar en centenario

que le tocará enfrentar en su segundo siglo de existencia

reafirmar sus valores fundamentales y difundirlos poner en valor la influencia que su actividad tiene sobre la vida cotidiana de las personas son algunos de los objetivos que se ha marcado la oit en diversas iniciativas que tiene enmarcadas como programa para este año

desde cualquier punto del planeta se pueden hacer aportaciones a los objetivos comunes que son promover los derechos en el trabajo fomentar las

social nuestra comunidad autónoma no debe quedar al margen de estas iniciativas nosotras y nosotros creemos que es una oportunidad para que euskadi se incorpore a este movimiento mundial el veintidós de enero comenzaron las fechas de celebración y estas van a continuar a lo largo de todo el año y a lo ancho de todo el mundo

participar con algún acto en la conmemoración del centenario de la oit eskerrik asko sánchez andrea erantzuteko san josé andrea zurea da hitza

señora sánchez me parece muy oportuno hablar en este pleno de control de un asunto tan importante como es la organización internacional del trabajo y hacerlo además en fechas

el departamento de trabajo y justicia y el conjunto del gobierno vasco no queremos dejar pasar la oportunidad de conmemorar un evento

queremos sumarnos y aportar nuestras ideas y reflexiones ya tuve la oportunidad de participar en la segunda conferencia nacional tripartita que celebramos a primeros de marzo en madrid

para impulsar la negociación colectiva y el diálogo social en euskadi

reflexiones sobre el futuro de la organización tripartita y la oportunidad que se abre este año para reforzar el organismo

sus fines y los logros conseguidos en estos cien años los actos del centenario comenzaron el veintidós de enero en ginebra con la presentación del informe elaborado por la comisión mundial sobre el futuro del trabajo trabajar para un futuro más prometedor y a lo largo del año se están sucediendo eventos en todo el mundo

para en colaboración con el instituto de sociología jurídica de oñati en esa localidad un congreso que contará con verdaderas autoridades académicas en la materia hemos elegido esa fecha porque como ha dicho usted muy bien señora sánchez es una fecha clave en la historia de la oit ese día será uno de los cuatro más importantes en las celebraciones a nivel internacional

recorrido mundial de veinticuatro horas el objetivo que nos hemos marcado es que las reflexiones y aportaciones que surjan en oñati puedan ser trasladadas a la conferencia que se celebrará en junio en ginebra partimos de la idea de que la regulación

entorno ni es universal ni está garantizada en el futuro

ante el futuro del trabajo contaremos con la opinión de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de euskadi conocen señorías la apuesta de este gobierno vasco por impulsar uno de los valores más importantes de la oit como es el tripartismo por ello hemos constituido la mesa del diálogo social mediante un decreto que tengo el orgullo podido publicar en este año conmemorativo también es constatable el decidido apoyo de este gobierno a la estrategia de desarrollo humano sostenible dos mil treinta de naciones unidas

es claro nuestro compromiso con el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos por otra parte debemos avanzar en un modelo de relaciones laborales más cooperativo

un primer nivel que asegure la estabilidad del modelo mediante acuerdos de ámbito sectorial y un segundo nivel

tenemos un reto importante como es el de favorecer procesos abiertos de diálogo social

no quiero finalizar mi intervención sin referirme al papel de la mujer y a la seguridad y salud en el mundo laboral en esto también estamos en línea con la oit y por ello creo que es fundamental que avancemos juntos y juntos trabajamos en euskadi

para elaborar ese nuevo contrato social y para que el futuro del trabajo sea un trabajo decente de calidad igual y seguro para todos y todas eskerrik asko eskerrik asko

señor lehendakari después de haber escuchado a su señoría y a su consejero de hacienda al que saludo decir esta mañana que todo va muy bien y que tenemos una perspectiva económica positiva entiendo menos lo que pasa con la ley de aportaciones que es de lo que le quiero hablar claro llevamos once años para ver si

el problema primero es que las diputaciones sean de distinto color ahora ya son todas del pnv después el problema fue que no había un acuerdo con el cupo se arregló el asunto del cupo

se hizo el informe que por cierto enfadó a todo el mundo y nada tampoco no hay manera de que salga el tema nos prometieron entonces que para diciembre estaba pero no estuvo

han puesto un parche para corregir algunos de los desajustes que genera el modelo

qué es lo que pasa cuál es el problema por qué es tan difícil sacar este tema adelante eskerrik asko

todo es mejorable y ese es el propósito de la acción del gobierno intentar mejorar aun cuando las cosas vayan en general razonablemente bien en relación con la ley de aportaciones usted sabe que todas las leyes tienen su importancia y todas las leyes tienen su peculiaridad pero usted sabe que esta no es una ley cualquiera

un alto grado de consenso institucional y político y que este debate concierne a los tres niveles institucionales del país y requiere una visión y ajustada de lo que es el conjunto de la realidad social y también institucional se trata por lo tanto de elaborar y aprobar una ley que tenga en cuenta las características socio económicas de cada territorio histórico proporcione un horizonte de certidumbre y estabilidad financiera

institucional y a todas las políticas públicas y con este objetivo trabaja el gobierno de la mano del conjunto institucional eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

la semana pasada el señor erkoreka su portavoz amagó con que ustedes iban a tirar la toalla y que la legislatura

no tiene usted pues casi ninguna de las leyes que comprometió

y además el argumento es que la oposición aquí le hace una pinza y que bloquea la acción de gobierno

y que usted viva solamente del parlamentarismo negativo sin un parlamentarismo positivo que pueda sacar las cosas adelante pero claro a la luz de la ley de aportaciones me lleva a hacer esa reflexión y digo pero realmente ese es el problema de que ustedes

de socialización de sus fracasos y de echar la culpa a todos los demás es creíble

pero cómo pueden ser los diputados generales de su partido

hay una maniobra orquestada para que esto no salga no verdad

quizás el problema es un problema de liderazgo que es lo que yo le reclamo y es un problema de un modelo claro y en este caso concretamente es un modelo que afecta a las bases de cómo consideramos nuestro país al gobierno vasco es verdad que parece que le sobra el dinero vemos los datos de ejecución que se publican

el año pasado más de quinientos cincuenta el año diecisiete oiga le han sobrado a usted mil millónes en dos años y mientras tanto ayuntamientos y diputaciones

asumir cargas y obligaciones que les hemos ido imponiendo en materia de bienestar de protección

y porque tienen un modelo que consigue efectos perversos cuanto más recaudas puede ocurrirte que dispongas de menos recursos y por tanto es un modelo

que ustedes denuncian en madrid competencias financiación dinero para el gobierno vasco

pero la incapacidad del gobierno para llegar a acuerdos no es culpa de la oposición su amago de tirar la toalla no es razonable y lo que tiene que hacer usted es ejercer

la culpa de lo que no sale adelante siempre a todos los demás por lo menos en este caso no es creíble

que su partido también se haya puesto en su contra eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor alonso por aclarar alguna cuestión en relación a lo que es

euskadi es la comunidad en el estado español con mayor índice de ejecución presupuestaria

al noventa y cuatro coma seis por ciento de la media por cierto la inejecución no significa señor alonso recursos ociosos o perdidos significa un ahorro en la gestión que se traduce en una menor necesidad de recurrir al endeudamiento

para que las elecciones autonómicas hubieran coincidido con las elecciones municipales forales y europeas yo tenía que haber disuelto el parlamento el pasado lunes y publicar el decreto el pasado martes estamos hoy aquí y ese es mi propósito

en todo caso también por matizar sí sería interesante que en relación a lo que es el calendario legislativo y el programa legislativo y su grado de cumplimiento usted analizara

de los anteproyectos de ley en consejo de gobierno y analizara también el grado de efectividad del legislativo que es el parlamento el legislativo que es el parlamento a la hora de aprobar

mire yo no oculto las dificultades usted las conoce en dos mil once cuando concluyó la vigencia de la ley de aportaciones el partido popular apoyaba al gobierno vasco y gobernaba la diputación de araba

pero contando con mayoría absoluta en el parlamento como contaba en aquel momento no logró ningún avance señor alonso eso sí ese mismo año dos mil once ustedes lograron avances en relación a la pinza que dice que yo denuncio no no yo denuncio una manera de hacer oposición no denuncia a la oposición yo denuncio

en el pleno de control anterior pero en relación a esa pinza ustedes lograron avances en el ayuntamiento de gasteiz cuando el partido popular pactó los impuestos municipales con eh bildu y otras iniciativas que pactó con eh bildu esta capacidad para acordar que ustedes practicaban es la que conviene recuperar mire hemos alcanzado consensos que conviene recordar como el pacto fiscal por ejemplo del año dos mil trece y es un buen modelo y

consensos relevantes primero en junio gobierno diputaciones forales y eudel aprobamos el análisis de las competencias propias y la financiación de los niveles institucionales de la comunidad

un análisis previo de la ley de aportaciones y segundo consenso el consejo vasco de finanzas acordó por unanimidad la creación de un fondo extraordinario dos consensos que
prevén y antesala la ley de aportaciones eskerrik asko eskerrik asko lehendakaria jauna

y a pesar de ello la tasa de paro entre la población joven es muy superior a la de entonces hagan cuentas y es cierto

macros pero también es cierto que aquí se da de manera más acentuada

capacidad y tenemos margen para poder frenarlo pero este gobierno carece de un plan para garantizar un relevo ordenado y un acceso de las personas jóvenes al mercado de trabajo en condiciones de estabilidad y calidad

el consejo económico y social vasco y llevamos tiempo advirtiéndolo llevamos tiempo advirtiéndolo que ustedes se conforman únicamente con objetivos

y es necesario ante el cambio de paradigma que estamos viviendo y hacerlo atendiendo además a nuestras características socioeconómicas esta además de ser una cuestión prioritaria es una cuestión sobre la que se debe actuar

de este país con semejantes condiciones laborales el propio consejo vasco de la juventud publica que la juventud

independizarse en solitario y tienen ustedes una ley de vivienda con mucho potencial que en este sentido no está desarrollándola y no sabemos muy bien el porqué y es que

y una vivienda digna son una especie en peligro de extinción eta egoera honen aurrean urkullu jauna etzipena da nagusi gazteen artean

eta etxebizitza el cuarto plan de juventud

con un eje específico centrado en la emancipación y en la autonomía de la juventud se plantean acciones en las tres áreas nucleares más demandadas por la propia juventud

de calidad para la adecuada formación con el objetivo de labrar un futuro mejor un mejor empleo o un empleo para poder desarrollar una carrera profesional

en este eje de la emancipación y la autonomía me centro especialmente en el ámbito del empleo el objetivo de esta legislatura es generar más y mejor empleo más en concreto se trata de incrementar las oportunidades laborales para la juventud facilitando la primera

en el área de empleo hemos establecido cinco objetivos estratégicos dieciocho líneas de actuación y cuarenta y dos iniciativas prioritarias

es lograr un mayor acercamiento y velocidad en el tránsito del mundo educativo al laboral el segundo objetivo es que más jóvenes cuenten con un empleo de calidad

con el fin de mejorar las oportunidades de empleo y trabajamos en la capacitación orientada a la mejora de las condiciones de empleabilidad la formación y la orientación socio laboral el tercer objetivo

centramos el esfuerzo en la información y en la comunicación con el fin de reducir la siniestralidad laboral y además aplicamos un especial foco a la vigilancia

el cuarto objetivo estratégico es que más personas jóvenes sean emprendedoras hemos reforzado el impulso y apoyo a todos los programas de emprendimiento y apostamos por la extensión de las vocaciones emprendedores entre la juventud

las iniciativas de economía social el quinto objetivo señor estarrona es lograr la inclusión laboral de los jóvenes en riesgo de exclusión este es un objetivo estratégico y sin duda uno de los pilares para evitar la exclusión de las

trabajamos de forma individualizada para mejorar la formación y la cualificación además de la orientación y el acompañamiento específico

más y mejor empleo para la juventud somos los primeros en afirmar que queda mucho camino por recorrer pero es importante creo yo reconocer el camino recorrido en estos momentos señor estarrona hay ciento diecisiete mil personas en paro

son menores de treinta años queda camino por lo tanto pero creo que es conveniente decir que la tendencia es positiva helburua da

como por ejemplo hablando de los esfuerzos realizados en la política juvenil no han logrado dar la vuelta a la situación y usted habla de fracaso

que usted reconociera también el camino recorrido y ese camino lo ha recorrido el conjunto de la sociedad porque esta es una prioridad de toda la sociedad y también por lo tanto del gobierno comparto señor estarrona que es necesario seguir mejorando la calidad del empleo juvenil y también que es preciso reducir

laboral ahora bien creo que es necesario reconocer el avance hace seis años como decía el veintinueve por ciento de las y de los jóvenes vascos se encontraba en paro

esa cifra se ha reducido casi a la mitad es del dieciséis por ciento

empleo y calidad de empleo la calidad depende señor estarrona en buena medida del nivel de la formación y cualificación por eso estamos impulsando

y la estamos extendiendo a la universidad y los resultados señor estarrona están siendo positivos la tasa de inserción laboral de las y de los jóvenes de formación profesional supera el ochenta y cinco por ciento y el tiempo medio de desempleo

con formación profesional se ha reducido a los cincuenta y seis días por otra parte la tasa de inserción laboral de las y de los jóvenes universitarios

y el tiempo medio de acceso a un primer empleo se ha reducido a seis meses

pero yo le he dado a usted datos y usted solo ha hecho aquí promesas los únicos datos perdón

no estoy siendo fiel a la realidad usted ha dado un único dato y es el del acceso al empleo y la tasa de empleabilidad pero en cuanto a la cualidad

y en la evaluación que recientemente han presentado ustedes en esta cámara

de su estrategia de empleo no recoge en ese sentido ningún índice cualitativo para poder la calidad del mismo por lo tanto hay objetivos que usted dice de palabra pero que luego no se recogen en esos planes no se recogen acciones concretas para poder lograr dichos objetivos y se quedan únicamente en palabras y ayer cuando yo estaba preparando un poco la interpelación después de un día un tanto tenso

en toda la legislatura o pregunta a mí me suena usted tiene mejor memoria que yo pero

en un momento que usted en ese intento de querer dibujar que las cosas van mejorando que este gobierno está siendo eficaz en las políticas de juventud que está llevando a cabo ha habido un momento en el que me ha parecido que usted está leyendo el cuento de urkullu en el país de las maravillas

usted hace mención al gaztebizhitza atarian hor ditugula datu batzuk

langabezi tasa apurtxo bat jaitsi dela baina kalitateari dagokionez okerrera goaz y hay crecimiento económico como decía el señor azpiazu y estamos viviendo

tiene una repercusión muy directa y los y las jóvenes de nuestro país son uno de esos sectores el dieciocho de septiembre de dos mil doce usted hizo la presentación de la candidatura que le llevaría a ser lehendakari por primera vez lo hizo aquí muy cerca usted tiene muy buena memoria como le digo en el caminante no sé si lo recordará

presentaron de la siguiente manera nuestro primer compromiso es poner en marcha un plan de empleo juvenil es urgente vamos a poner todos los medios en formación de empleo activar contratos en prácticas y los contratos de formación fomentar el autoempleo ofrecer becas de internacionalización y dinamizar lanbide vamos a comprometer iniciativas para llegar a veinte mil jóvenes para ofrecerles una respuesta para acceder a un empleo

en la actualidad y en el marco de esta décimoprimera legislatura las políticas de juventud son una prioridad para el gobierno vasco y como tal prioridad se ha planteado como segundo objetivo de país

es aquel que toma las decisiones adecuadas ajustándose a la realidad en cada momento y si usted considera que sus políticas

pues consecuentemente concluimos que la situación en dos mil doce y la de dos mil diecinueve es la misma es la misma y por lo tanto las cosas no han cambiado y es que ustedes una y otra vez

ustedes obtienen los mismos resultados y por eso concluimos que el principal motivo de que la situación no haya cambiado es por la ineficacia de las políticas dirigidas

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor estarrona con todo el respeto y consideración

le ha impedido el atenderme a mí en todas las respuestas que le he ofrecido señor estarrona porque le he ofrecido todos los datos

dena dela zuk sí señor casanova alguna cuestión sí ya

la tasa de incorporación al empleo de los jóvenes menores de treinta años está de la tasa media de la población general y esta no es una afirmación del gobierno vasco señor estarrona sino la conclusión de la universidad del país vasco

por lo tanto rogaría que se atienda a la realidad a los datos objetivos año dos mil trece el veintinueve por ciento de la juventud estaba en paro año dos mil dieciocho ha bajado al dieciséis por ciento el único fracaso señor estarrona y así lo reconozco sería que pensáramos que el problema está resuelto

ni mucho menos en absoluto tenemos que lograr más y mejores oportunidades de empleo para la juventud beraz bestetik

y control y siempre con el objetivo de la mejora continua

también las de juventud y el hecho de adaptar las políticas a los nuevos tiempos no quiere decir que hayan fracasado el fracaso en realidad se daría si no fuesemos capaces de adaptarlas al tiempo actual y creo que el tiempo actual es otro diferente al tiempo del inicio de la legislatura o al tiempo de la legislatura anterior

izugarriak señora ya le he dicho que este asunto no tiene nada que ver ni con la igualdad ni tampoco con la conciliación es un sector feminizado como el conjunto de la administración y la administración general particularmente que también es feminizado no hay nada especial aquí que no concuerda en el resto de las administraciones públicas

esta no es una cuestión insisto que tenga nada que ver ni con la conciliación ni con la igualdad lo que sí tiene que ver conciliación y con la igualdad es la apuesta que el gobierno vasco ha hecho por los permisos de parentalidad por los permisos de maternidad y de paternidad y en este sentido sí le anuncio que mira en la próxima mesa general se va a hacer una propuesta para la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad para que efectivamente ambos progenitores puedan gozar plenamente y en las mismas condiciones de los

están bajo su dependencia eso sí que es conciliación eso sí que es efectivamente

tenía verdadero interés en sustanciar esta pregunta porque bueno usted sabe que

efectuó hace unas semanas abriendo la posibilidad de un hipotético adelanto electoral no sé si a propios pero sí a extraños sorprendió y generó

abierta por usted es verdad que pocas horas después incluso hoy mismo

quizás es casi como compartir corporativamente entre dos portavoces

a usted le corrigieron pero más allá de estas consideraciones a mí lo que me gustaría es conocer por qué

en el gobierno vasco con su experiencia con su dilatada experiencia política no creo que de puntadas sin hilo e intuyo que más allá de otras consideraciones cuando usted

de un adelante electoral es perfectamente consciente del debate que eso va a generar y me gustaría saber si tan débil se sienten ustedes como para tener que recurrir a estas estrategias

y usted mismo se ha respondido el artículo cincuenta de la ley de gobierno dice que el lehendakari podrá bajo su responsabilidad y previa deliberación

la semana pasada aquí mismo a preguntas de los profesionales de los medios de comunicación dijo que no era su propósito en absoluto hacer uso de esa atribución que por otra parte la ley reconoce

por tanto la cuestión está zanjada roma locuta causa finita autorización o no desautorización

pero sí es verdad que tiene una dimensión importante mire en un momento como el actual de cierta inestabilidad política en el conjunto de españa

incluso al presente de nuestros designios políticos yo creo que tenemos que tener quizás un poco

a la hora de manifestarse en estos términos todos sabemos el momento complicado por el cual atraviesa el gobierno vasco

paganos una inestabilidad política que ha provocado además otras derivadas

incluso a contribuir a colaborar en la estabilidad de españa en el congreso de los diputados fíjese usted donde estamos lo cual también provoca

el escenario político puede estar abocado a un cambio pero esto lo provocaron ustedes esa inestabilidad

también una inestabilidad provocada por ustedes en exclusiva en el propio parlamento vasco ustedes iniciaban la legislatura no solo con el apoyo del partido socialista que ese es fácil

sino que también tuvieron el apoyo del partido popular que rompieron ustedes esa estabilidad

por cierto dónde está esa ponencia también ponencia

legislatura la mal llamada ponencia de memoria también paralizada es decir su gobierno que nace con una vocación de estabilidad

de aportar estabilidad ustedes solo se han encargado ustedes solos se han encargado de renunciar a esa estabilidad

no se legisla este parlamento no aprueba leyes porque el gobierno tampoco tiene capacidad de impulsar y yo lo que quiero es aprovechar estos últimos segundos

estabilidad es fundamental para la sociedad y para nuestra economía pero esa estabilidad solo se puede ganar o solo se puede recuperar desde la humildad y el gobierno vasco aunque sea del pnv también tiene que tener humildad desde la ambición de país yo entiendo que ustedes tienen mucho poder y están muy cómodos pero hace falta ambición para afrontar el futuro con más garantías

reformas busca de entendimiento entre diferentes lo otro

ya le he contestado no tengo ninguna intención en debatir con usted sobre alcance y contenido de unas declaraciones que se produjeron en euskera y que usted seguramente no entendió directamente y que los conoce a través de una traducción burda y manipulada

sobre la continuidad y la estabilidad el lehendakari ha hecho un pronunciamiento aquí en esta tribuna esta misma mañana

con el entendimiento con las fuerzas políticas de la oposición y la humildad fíjese hasta qué punto la ejerzo que usted me puede llamar frívolo sin ninguna dificultad y yo no le voy a contestar mire

cometido un error durante todos estos meses años es el de tener una hoja de ruta equivocada

conllevaba primero que apareciera un inversor y segundo que hubiera dinero público para apoyar la realidad es que la hoja de ruta correcta es que primero con dinero público se compren los activos para después poner esos activos a disposición de un inversor a día de hoy con su hoja de ruta

y el segundo error que van a cometer ahora es dejar que ese inversor lo seleccione el mercado que sea el mejor postor que sea el mejor postor los anteriores inversores se encontraron una empresa con cuarenta y seis millónes de euros de beneficio en tres años y cincuenta y seis millónes de fondos propios tres años después dejaron un agujero de más de cien millónes de euros y la plantilla en la calle han sido denunciados por los accionistas minoritarios por administración desleal uso de información privilegiada adopción de acuerdos abusivos actos contra la libre competencia delito de apropiación indebida y delito societario

inversores si queremos que los nuevos inversores no repitan lo mismo necesitamos tener garantías de que van a actuar correctamente

que esto no se repita usted dice son privados y si no quieren contar con nosotros no contarán pero se van a hacer esos inversores privados con los pocos activos

y las instalaciones y se van a hacer con ellos al mejor postor al precio más bajo la única solución para evitar eso para

aunque sea con otra plantilla es que el gobierno puje por esos activos que los compre y que los ponga a disposición de los posibles inversores

sus compromisos se recuperen esos activos esos terrenos y esas instalaciones

que puedan hacer ustedes en el futuro se haga con garantías de retorno

señora tapia hemos perdido a la plantilla hemos perdido ya a la industria auxiliar y si ahora perdemos los activos

inaceptable será inadmisible que un gobierno

ya no una vez sino dos veces que suceda el mismo problema ya no vamos a plantear ninguna otra solución pero que al menos se hagan con los activos es el mínimo que se puede exigir a un gobierno para que muestre un mínimo de compromiso

y con la comarca a la que llevan dos años diciendo defender pero que hasta ahora no han hecho nada eskerrik asko becerra jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea hoja de ruta adecuada o no adecuada es su su opinión hasta ahí no voy a seguir los inversores me dice los elige el mercado no no los elige el mercado los elige el administrador concursal en un proceso concursal no tergiverse se realiza se abre un periodo en el cual diferentes inversores

quien decide a quien se los va a adjudicar no el mercado no al precio más bajo se tiene en cuenta el precio el compromiso del proyecto el número de personas que se van a volver a emplear se tiene en cuenta todo eso y usted mire

el caso del concurso de acreedores en lagun artea había dos proyectos bien diferentes con empleos bien diferentes uno era mucho más elevado en precio que

no tiene usted más que mirar a quien se le adjudicó por tanto no tergiversemos porque existen realidades que nos hacen ir a donde se encuentra la verdad y no a lo que uno quiera decir en esta tribuna los inversores previos cómo actuaron o no actuaron

privada evidentemente por supuesto que vamos a exigir responsabilidades a los administradores a los inversores a los que ejercen su responsabilidad

en todos los órganos por supuesto porque es su empresa y en este momento la responsabilidad de

privados por supuesto de los previos por supuesto y en este sentido nosotros estamos abogando por una hoja de ruta que a usted no le gusta no tiene por qué compartirla conmigo pero que en estos momentos es la única posible y la única real y por cierto usted sabe muy bien qué es lo que bruselas dice y no dice pero es que los ha dicho por carta

y dice la comisión se reserva el derecho de volver a examinar los hechos cuando ha cerrado el procedimiento si surgen nuevos elementos pertinentes en particular

directa o indirectamente a la empresa la naval o a otra empresa que adquiriese sus activos productivos creo que más claro no se puede ser eskerrik asko eskerrik asko

la comunidad vasca es la segunda con mayor gasto por persona dependiente al año

por detrás de cantabria ustedes subieron ese titular a las páginas oficiales del gobierno normal lo que no contaron es que ese mismo informe decía que

entrecomillo porque cito textual lo más probable es que te den un dinerillo

tampoco dijeron que tenemos tres años para resolver nuestra lista de espera que hay miles de personas en lo que llaman un limbo

que en relación a los datos de otros lugares del estado con los que suelen suelen gustar compararse porque siempre ganan es

es que cada vez es más evidente que existen dos euskadis que se avanza en dos velocidades distintas una euskadi para el bienestar de una minoría al servicio de los intereses de unos pocos disimulada en un gran escaparate adornado con grandes titulares grandes eventos números macro que dejan

para mantenerse en el poder no para el bien común que

hay otra euskadi una activa solidaria que es motor y protagonista de la conquista de derechos la que avanza por el empuje de la gente joven que se implica en el cambio climático por el de las mujeres que salimos masivamente a la calle por el de personas mayores que defienden

o por el de trabajadoras y trabajadores de la naval que luchan por el mantenimiento del empleo esa es la euskadi de ciertos barrios o comarcas de ciertas áreas de nuestra sociedad

que tiene peores servicios y que no forman parte de las prioridades del gobierno y es de esas señora artolazabal de la que yo hoy quiero hablar de la euskadi de la que usted nunca se acuerda cuando hay que tomar decisiones estratégicas redistribuir riquezas o asegurar la calidad de vida

porque falten recursos sino porque hay una gestión cuanto menos mejorable es evidente esta mala gestión en la que

desconocimiento desinformación listas de espera y a cambio algunas ayudas para que

en casa sin hacer ruido o nos quedemos en una lista de espera y no accedamos ni a prestaciones ni a servicios en el llamado limbo de la dependencia me gustaría que hoy hablásemos en un diálogo sincero con intención honesta de mejorar

y desde ahí le pregunto señora artolazabal en el gobierno del bien común están conformes en cómo avanza el sistema de dependencia según el centro empresarial de atención a personas poco sospechoso de ser contrario al gobierno o favorable a elkarrekin podemos hay setenta y ocho mil ochocientos once personas reconocidas como dependientes de las que

están en el limbo de la dependencia personas a las que se le ha valorado se les reconoce que tienen una necesidad

de ocho mil trescientos setenta y cuatro personas diagnosticadas como dependientes en primer grado y cinco mil cuatrocientos veinte en grado dos y tres esto en araba por ejemplo significa que hay ciento quince personas a la espera

ochocientos treinta y seis personas de las que más de trescientos son personas totalmente dependientes en bizkaia según la diputada de acción social no hay lista de espera hay proceso de reasignación de plazas

será porque solo se les da la prestación si renuncian a la espera de asignar una plaza nosotras hemos logrado

ya es un dato pero según estos informes sabe cuánto se estima que al ritmo actual tardaría euskadi en dar curso a todas las demandas y dependientes que están en la lista de espera tres

por si no se han dado cuenta quieran o no quieran las familias en particular las mujeres

para que sus familiares tengan una atención digna es esto justo es esto la buena gestión de la que siempre hablan

valoradas datos que hemos averiguado gracias a nuestra presencia en las instituciones pero que no son públicos en ningún lado por lo menos que te permita hacerte una visión global como digo la falta de datos también es un dato el de estas cuatrocientos cuarenta y dos personas que por ejemplo han sido rechazadas en bizkaia en el año dos mil diecisiete solo cinco fueron por incumplimiento de requisitos según el observatorio estatal de la dependencia en el año dos mil dieciocho euskadi estuvo

insisto es esto buena gestión continúo como usted bien sabe la ley de dependencia establece un catálogo de servicios y recursos en los que hay prestaciones económicas concretamente la prestación para el cuidado

y que dice expresamente que debe concederse de forma excepcional y qué nos encontramos

para cuidados en el ámbito familiar sabe cuánto hay en otros ámbitos no mucho más de siete mil por ejemplo con sesiones de ayuda a domicilio o de plazas en centros de día es decir

es una realidad de hecho todos los informes coinciden las políticas de dependencia en euskadi aun estando a la cabeza del gasto social en dependencia son ineficaces concretamente invirtiendo casi un diez se cubre un seis insisto buena gestión continúo porque no es lo único

en el estado español hay una sola ley de dependencia y sin embargo diecinueve modelos de atención dieciséis comunidades autónomas y los tres territorios históricos en la comunidad autónoma del país vasco yo sé señora artolazabal que a las vascas nos gusta

vulnerar el derecho a la igualdad porque no vas a tener los mismos recursos si vives en gasteiz en zornotza o en pasaia estoy convencida me pregunto cuál es el papel que usted que el gobierno que debe liberar estos servicios

última de qué manera asegura a la ciudadanía vasca ese derecho a la igualdad y ya voy a ir terminando la principal preocupación de la ciudadanía en euskadi es el empleo

sabe cuánto retorno cuánto dinero cuántos puestos de trabajo sostenibles y deseables para una euskadi de primera se están dejando que se vayan por el desagüe señora artolazabal

empleos que no solo son deseables porque se dirigen a cuidar y a cuidarnos a todas sostenible es un empleo que no contamina y sobre todo es un empleo que ni se deslocaliza ni corre el riesgo de sufrir ninguna opa por ninguna multinacional pero sin embargo y aunque no hay ni una sola razón política para oponerse a la creación de empleo en el cuidado de personas estamos

o madrid en creación de empleo resulta que cuando negocian el cupo que nadie entiende porque no es transparente nunca escuchamos a nadie del pnv decir que se están negociando

y que desde euskadi se han vendido como asumidos por las diputaciones se hubieran creado al menos setecientos setenta y uno empleos nuevos directos y deseables setecientos setenta y uno empleos que ustedes han decidido dejar de crear y eso implica que hoy se hubieran podido atender a más de tres mil personas

no una invitación para que pasen a la acción porque como le decía al principio señora artolazabal somos lo que hacemos para cambiar lo que somos y por lo tanto

que dicen ustedes preocuparse por la corresponsabilidad y los cuidados este ámbito entre también a ser una prioridad más allá de los grandes titulares porque la ciudadanía vasca no merece una euskadi ni en dos tiempos

egiten jarraituko dugu queremos construir el bien común de verdad y con conciencia es por ello que le preguntamos en el marco del sistema de servicios sociales qué planes tiene usted desde el gobierno para mejorar la atención a las miles de personas dependientes que viven en euskadi besterik ez mila esker

yo no sé en qué euskadi vive señora guanche desde luego no es la que otros

y a la que se acercan para aprender y mejorar en sus comunidades autónomas y en sus ciudades euskadi destaca positivamente

en sus inversiones como en su gestión a pesar de lo que usted ha querido trasladar hoy esta mañana aquí desde las administraciones vascas destinamos como bien decía

por persona tan solo superados con cantabria con esos ocho mil seiscientos cincuenta euros

en las últimas décadas especialmente en los últimos quince años las políticas sociales vascas destacan por su iniciativa en derechos en recursos en servicios

sabemos que no hay construcción social sin cohesión social y no hay cohesión sino atendemos con justicia con dignidad con calidad

y es lo que estamos haciendo aquí en euskadi la atención a la dependencia constituye un reto para euskadi y por ello nuestras políticas se basan en el envejecimiento activo en la inclusión en una buena gobernanza en una plena participación y en el máximo confort para las personas dependientes

pero queremos avanzar y mejorar constantemente estamos recogiendo y materializando el nuevo paradigma en el que nos movemos y para ello planificamos centrándonos en la persona

y en la ética en la gestión de todos nuestros recursos el marco normativo es la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia así como la ley de servicios sociales de euskadi responde al reto de atender a las necesidades de personas con especial vulnerabilidad y que requieren apoyos para alcanzar esa mayor integración y ese mejor cuidado tanto en el promedio de gasto por dependiente como por habitante

del estado como consecuencia del componente de servicios económicamente más caros señora guanche porque en euskadi

en los recursos sociales y porque también la tasa de cobertura es superior a la que se da en otras comunidades autónomas la interpretación

es única y conjunta tenemos competencia en el área social y por eso organizamos y gestionamos de una forma coordinada y lo hacemos desde nuestra ley de servicios sociales y desde el decreto de cartera y de prestaciones del sistema vasco de servicios sociales

que comenta y valora las políticas relacionadas con la atención a la dependencia

también lo hacen otras series de informes y otra serie de índices como es el de la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales una entidad de prestigio y también reconocida en el sector y su estudio es el único que

que mide y evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos del sistema de atención a la dependencia y ese informe que se realiza desde el año dos mil doce

la cobertura de la dependencia en euskadi en dos mil diecisiete pasó de atender al ocho coma seis por ciento de la población al diez coma seis por ciento cuando la media estatal está en el ocho coma cinco por ciento esto muestra el esfuerzo que realizamos el gobierno vasco las tres diputaciones forales

y digo esto para que se tenga en cuenta que el nivel alcanzado en euskadi es muy superior a la media según los datos de la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales otro de los ámbitos en los que la propia presidenta del círculo empresarial de atención a personas al que usted se refiere a ese informe

insiste en la importancia o lo importante que es que se potencie la coordinación sociosanitaria y en euskadi estamos en ello

la receta electrónica en las residencias tenemos un plan estratégico sociosanitario dos mil diecisiete dos mil veinte en el que se están priorizando esas iniciativas

consideramos fundamental y estratégico desarrollar esta coordinación ya que de la misma derivan mejoras sustanciales en la calidad de vida

como usted bien sabe siendo un reflejo de la apuesta que aquí se hace en la prioridad que se da a la atención a la dependencia y como le he dicho anteriormente invertimos porque pagamos

para nosotros es una prioridad y las personas que viven en este país también

en cuanto a la red local de servicios sociales en euskadi se cuenta con un profesional

el gasto en servicios sociales por habitante en euskadi es de seiscientos once euros frente a los doscientos cincuenta y uno en valencia o trescientos noventa y dos en aragón dos y tres veces más según el caso algunos informes generalizan y afirman como es

porque nosotros tenemos la competencia en materia fiscal pero el estudio no tiene en cuenta la excepcionalidad vasca porque sí que recuperamos esos retornos

y en buena parte del informe no nos vemos reflejados euskadi tiene una puntuación de excelente en su tarea de atención siete coma cinco puntos sobre diez y esa la única comunidad que lo consigue eso dice mucho y bien

pero todavía señora guanche nos queda mucho camino por delante es evidente de la buena salud que goza la atención a la dependencia en euskadi pero todavía nos queda mucho por recorrer

es algo en lo que estamos trabajando desde el inicio de la legislatura hemos impulsado el decreto de residencias para personas mayores estamos trabajando en una estrategia de personas cuidadoras

y desde el punto de vista sociosanitario estamos desarrollando como le decía

se trata de una apuesta fundamentada en un sólido consenso dentro de una red compleja competencial como es la nuestra y que en este momento estamos definiendo el decreto de gobernanza sociosanitaria este informe recoge en el ámbito de la teleasistencia las nuevas

si de la lectura de ese informe usted ha destacado cosas también hay que destacar que una de ellas es que dice que está poco desarrollado y que además las nuevas tecnologías deben ser implementadas en el ámbito de la dependencia para mejorar la calidad de servicio y euskadi

y estamos en pleno proceso de digitalización del anterior sistema analógico del servicio de teleasistencia betion

y a pesar de la buena situación que muestran los distintos indicadores y los distintos informes que se han elaborado no solamente el de gerokon que por cierto nosotros no trasladamos ninguna información a los medios de comunicación no sé de dónde sacaron el titular ni de dónde sacaron la información pero no fuimos nosotros señora guanche

contando con todos y aquellos datos informes y opiniones cualificadas que contribuyan a mejorar nuestro servicio de dependencia mila esker

por partes que tengo muchos papeles encima de la mesa usted no sabe en qué euskadi vivo por eso digo que a veces

yo como sabe soy trabajadora social de formación y además en estas semanas previas a esta interpelación he andado preguntando a profesionales del sector que por suerte conozco bastantes esta información está contrastada y no he tomado de referencia solo el informe del ceaps he tomado el del observatorio que usted también nombraba además he tomado

y además he estado tomando de referencia también el informe del dicho esto lo que sí es obvio es que ustedes no ven lo que no quieren ver es una postura legítima no seré yo quien le diga pero que sepan que aunque no la vean

usted dice que hay datos que destacan efectivamente yo le voy a contrastar

en esta ruta nombra a euskadi en cuatro pasos la primera la que he nombrado antes

la segunda para decir que el servicio más prestado es la teleasistencia servicio que luego en el interior del informe define como que abarata e impide la creación de puestos de trabajo la tercera en la que

como si fuera por inspiración divina del gobierno porque ustedes y retomo el discurso anterior

es hablando de donde más trabajo se crea dice textual donde más trabajo se crea con el mismo dinero se destina más atención a la dependencia

más del doble que en navarra o país vasco entonces

al global lo que está bien se reconoce bien hecho lo que está mal se tiene que reconocer mal hecho

deficiencia económica yo le voy a leer textual una parte del informe del observatorio de gestores de servicios sociales que usted ha nombrado en su intervención

denota así voluntad inversora pero la eficiencia del gasto público es un factor que requeriría mediciones más allá de la mera agregación de euros

que más gasto tienen y en las que se observa una menor eficiencia de los recursos estos no me lo estoy inventando lo estoy leyendo textual del informe bien sigamos usted me traslada

se crea empleo y se crea de calidad por cada cien euros de gasto público en dependencia en el año dos mil dieciocho se recuperaron directamente

la clave está en el modelo de prestaciones y servicios para la optimización del gasto público la diferencia clave es que si ustedes invierten en ayudas para que la gente se quede en su casa eso no retorna

ni retorna desde luego en calidad de la atención usted me habla de excelencia yo lo siento pero le niego la mayor

no me hable de eficiencia ni de excelencia usted me habla

o por ejemplo en el que en la anterior evaluación de la estrategia no se había conseguido ni un solo objetivo en lo referente a los colectivos diana

usted me habla de que no se ven reflejadas en buena parte del informe y esto es lo habitual en su gobierno solo se ven reflejadas en aquellas cosas bien paradas pues ya lo siento señora artolazabal pero como dice la ley de servicios sociales usted tiene el mandato del desarrollo normativo y la acción directa

a los efectos de la presente ley se entiende por acción directa la competencia de ejecución de prestaciones y servicios y ustedes le guste más verlo o no verlo

para el derecho reconocido que tiene la ciudadanía de este país y tienen que hacer algo para solucionar esos tres años de media que tardaríamos a este ritmo y con la marcha automática que tienen puesta en solucionar a toda esa gente que ahora mismo se encuentra en un limbo teniendo un derecho reconocido besterik ez mila esker

se quede en casa sino que nosotros invertimos para ofrecerle los mejores recursos y los recursos que les proporcione la mayor calidad porque como usted bien sabe y sabe

con trabajadores sociales y con profesionales que trabajan en el ámbito de lo social porque parece que usted es la única que tiene esa potestad

cada vez que se pregunta y se encuesta a las personas mayores quieren estar en sus domicilios y para eso lo que tenemos que hacer es ofrecerles recursos
ofrecerles prestaciones guanche andrea entzun mesedez ofrecerles servicios para que las personas puedan estar

de ello porque estamos además dando seguridad a esas personas

yo he valorado diversos datos que en general hacen positivo y reconocen el trabajo que se está realizando en euskadi que parece que a usted le molesta

en febrero del año dos mil diecinueve el número de solicitudes de valoración de la dependencia ascendió en euskadi a ciento dos mil cuatrocientos ochenta y cinco personas

obtuvieron una resolución de valoración y eso por tanto para la práctica totalidad de las solicitudes

de esas resoluciones del total de personas beneficiarias con derecho a prestación

representa el setenta y siete por ciento de las resoluciones

pero hombre también estaría bien que reconociera todo el trabajo que venimos haciendo no solamente en esta legislatura

un camino que ha recorrido el conjunto de la sociedad pues es una prioridad para todos señora guanche las políticas sociales en este país es una prioridad desde el punto de vista de lo social desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la salud

un total de sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve personas son beneficiarias en la práctica

y las diputaciones forales son un ejemplo a seguir tanto en la valoración profesional de la dependencia como en la calidad de sus profesionales encargados del control de la inspección de los centros en el número y en la calidad de recursos que ofertan y que financian

una situación que reclamamos de forma repetida en el ministerio son que las diputaciones son las que están asumiendo la mayoría del gasto en dependencia en euskadi mucho

y esto como usted bien sabe tiene su origen en la reforma que se realizó en el año dos mil doce en la que el estado dejó de asumir su compromiso de financiación

y como le comentaba antes dentro de las otras generalidades que aparecen en el informe y que no pertenecen a la realidad vasca tiene que ser

ya que en euskadi constituye un referente internacional en el modelo de teleasistencia a la dependencia y estamos incorporando esa nuevas tecnologías que aparecen

estamos incorporando por ello la digitalización centrada en la persona y esto lo han reconocido desde el cabildo de lanzarote que estuvimos esta misma semana con ellos hasta gobiernos como escocia irlanda del norte uruguay chile alsacia

nuestro departamento por tanto es el titular del servicio de betion está trabajando

en el que la coordinación entre los servicios sociales y el de salud es muy importante el hecho de que en los diferentes informes euskadi obtenga

puestos del ranking de buena atención a la dependencia pone de manifiesto el compromiso que hacen las instituciones vascas

que como hemos visto todavía nos queda trabajo por delante pero sí que es verdad que se están haciendo muchas cosas y que se están haciendo muchas cosas bien insisto tenemos un camino por recorrer pero también tenemos un camino

andado y es verdad que no solamente todo se hace con dinero esto lo he repetido yo muchas veces y que hay que saber

y es verdad que tenemos que hacer un análisis de la eficiencia de los ingresos y de la inversión que se hace en este país

como parte de esa generación que tenemos la sensación de que nos están robando el futuro

somos la generación mejor preparada y sin embargo nuestras expectativas son muchísimo peores que las de nuestros padres madres y también son peores

han quedado secuestradas en euskadi porque la precariedad está instalada en todos los ámbitos de nuestras vidas en los ámbitos de las vidas de las mujeres ser joven en euskadi significa incertidumbre básicamente si podremos pagar los estudios si tendremos un empleo de mierda el día de mañana o si no lo tendremos jamás si nos echarán a la calle porque alguien con los bolsillos llenos diga que salimos caros si podremos emanciparnos o si podremos formar

las dificultades de la juventud para desarrollar un proyecto de vida son sin duda estructurales no son la coyuntura económica o del actual mercado de trabajo porque antes de la crisis el alto desempleo juvenil la temporalidad de los contratos y la dificultad de acceder a una vivienda ya estaban ahí y la única respuesta

que apenas han podido poner pequeñas tiritas para tratar de revertir algunas de las consecuencias negativas de un sistema que se desangra de arriba abajo

permítame recordarle señora artolazabal que la juventud somos el presente somos parte de esta sociedad y sin embargo el noventa y cinco por ciento de las políticas de este gobierno nos perjudican o en el mejor de los casos nos ignoran las condiciones para que ser joven en euskadi sea una situación de riesgo económico y social las decisiones políticas que se han tomado los recortes el desmantelamiento de los servicios sociales o las reformas laborales para flexibilizar el mercado de trabajo han hecho que las personas jóvenes de hoy

no tengamos perspectivas reales de tener un proyecto de vida que se corresponda con las oportunidades que ofrece euskadi y la realidad señora artolazabal

siguen tratando de parchear una situación estructural usando las mismas recetas que han demostrado ser un auténtico fracaso se ha preguntado usted alguna vez

a mirado usted alguna vez a la raíz del problema en vez de a la punta del iceberg señora artolazabal porque no hay soluciones fáciles a problemas difíciles

y pasar a revisar el impacto de las políticas en general en la juventud ha analizado su gobierno cómo afecta a los jóvenes la privatización de la escuela pública por parte de ese propio gobierno alguien del gobierno se ha parado a pensar cómo nos dificulta la emancipación a los jóvenes

tiene usted en cuenta señora artolazabal el número de jóvenes afectados por los recortes en la renta de garantía de ingresos

de la juventud tiene su gobierno datos de cuántos jóvenes a pesar de tener la formación necesaria tendrán que trabajar en el turismo o en la hostelería

de su gobierno sigue destruyendo empleo de calidad cuando se pospone una y otra vez la imprescindible ley del cambio climático

transición energética y ecológica que precisa nuestra economía ha protestado usted en su gobierno por impedir que sectores y empleos sostenibles del futuro

si este gobierno apuesta por mantener sin cambios sectores que dentro de veinte años no existirán o que en el mejor de los casos estarán en declive y una y otra vez pospone y ralentiza la necesaria transformación de nuestra industria y de nuestro tejido productivo a los retos climáticos tecnológicos

al futuro de una generación entera porque llegaremos tarde deprisa corriendo y sin planificar a una transición que es inevitable y que va a penalizar

son ustedes los que llevan más de treinta años tomando decisiones en este país los que han construido un muro que las personas jóvenes no podemos saltar

la oportunidad de desarrollar tu proyecto vital depende en gran medida de los recursos de tu familia y del barrio en la comarca en la que nazcas dese una vuelta conmigo

cómo y sobre todo de qué viven los jóvenes menores de treinta años y no se ría señora artolazabal porque eso no es gracioso no es gracioso esto

en este modelo son conservadores por naturaleza y el inmovilismo su poca audacia para leer el futuro que nos ha tocada vivir está hipotecando

y es por ello que le preguntamos hoy señora artolazabal qué valoración hace usted sobre el impacto de las políticas del gobierno vasco en juventud porque lamentablemente

pensando en las consecuencias que tienen para las personas jóvenes y para nuestro futuro ustedes

porque el cortoplacismo la tiranía electoral y la falta de visión y proyecto de futuro hace que las decisiones de su gobierno

y en asegurar los beneficios de una minoría sin embargo se olvidan de construir un presente y un futuro en el que la juventud podamos desarrollar nuestro proyecto de vida y por eso hace falta un proyecto de país que no se olvide de nosotras que no se olvide las personas jóvenes

un proyecto de país que lamentablemente ustedes no tienen porque ustedes no son capaces de entender que toda decisión estructural toda política de este gobierno tiene un impacto real en la vida de las personas jóvenes desde la política industrial la climática o las infraestructuras me da igual cualquiera

por su parte mala gestión y por eso estamos saliendo a las calles y reclamando

y que ustedes nos lo están negando con sus políticas para que ustedes que llevan décadas al mando de este país nos escuchen y actúen de una vez eskerrik asko

se ha dejado señor bollain el bolígrafo yo le decía antes a la señora guanche de que parece que son los únicos que

que tienen o que necesitan los jóvenes en este país y los demás lo hacemos todo a la contra no planificamos o las decisiones políticas solamente las hacemos para fastidiar bueno eso es lo que usted me ha dicho y que además de todo eso es un auténtico fracaso bueno cuando

trasladarle cuáles son los datos objetivos de lo que está pasando en euskadi con los jóvenes que desde luego tengo clarísimo

que tenemos que atender pero si llevamos gobernando

van a votar y allí nos retrataremos todos y allí iremos cada uno poniendo encima de la mesa cuáles son

opina sobre ellos parece parece según las encuestas que lo que estamos haciendo nosotros a la gente le gusta y está dando resultados con lo cual

ustedes y nosotros en breve lo que nosotros dentro de las políticas de la promoción de la juventud estamos planteando y la pregunta que usted me hace

todo mejorable pero desde luego son eficaces y positivas porque ha habido cambios en la situación de los jóvenes porque además ellos mismos

y que por tanto ellos están con una expectativa más favorable y esto lo hacemos todos de una forma conjunta dentro de lo que es el gobierno aglutinada como se trasladó en la comisión en base

la situación de los jóvenes en euskadi tenemos diferentes iniciativas

y para eso están trabajando más de treinta y nueve direcciones de este gobierno

de la cultura de las políticas sociales de una forma coordinada

dos mil treinta establecidos por las naciones unidas y en ello estamos y somos conscientes de que la crisis ha afectado de manera más directa al colectivo joven y que la coyuntura pos crisis va a ser distinta a los que hemos conocido hasta ahora porque los demás también tenemos jóvenes yo también tengo una hija que va a hacer diecinueve años y espero que tenga un futuro prometedor en este país que si tiene que salir fuera

a formarse tanto como persona como a nivel profesional pero que luego revierta su conocimiento en euskadi y para eso estamos intentando implementar políticas los jóvenes vascos tengan empleos y tengan empleos de calidad que nos permitan seguir creciendo como país para contribuir a este país a tener ese estado del bienestar que nos hemos dotado y que queremos seguir manteniendo en la actualidad nos encontramos como le decía en una recuperación económica y el producto interior bruto parece que tiene una tendencia positiva y mantenida los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo han aumentado un dos coma cuatro por ciento en relación al mismo trimestre del año anterior y los datos son positivos pero en la realidad

y el reto que tenemos es que las medidas que diseñamos sean efectivas a esa nueva realidad desde el punto de vista del empleo observamos que la tasa de desempleo en la población joven aunque baja todavía no está a los índices a los que nos gustaría que estuviera

con la tasa de desempleo juvenil más baja y por otro lado la tasa de paro de larga duración entre los jóvenes que indica el porcentaje de la población activa entre dieciséis

y dos mil dieciocho en el dos mil quince esa tasa estaba en el diez coma siete

más de la mitad en tres años señor bollain el empleo a tiempo parcial está más extendido entre los jóvenes que en la población ocupada del diecisiete coma siete por ciento

trabajando con los diferentes agentes sociales pero como ya le he comentado en otra ocasión nosotros aparte de crear empleo creemos que ese empleo sea de calidad

hay una cosa positiva la diferencia entre las tasas de hombres y mujeres

la tasa de actividad del conjunto de la población de euskadi es del cincuenta y seis coma cinco por ciento en el dos mil dieciocho

entre los treinta y los treinta y cuatro años la situación varía sustancialmente y nos encontramos con que la mayoría de las personas que forman parte de este grupo forma parte de la población activa

la tasa de actividad del colectivo de treinta a treinta y cuatro años es del noventa coma seis por ciento

la ocupación juvenil aumenta con el nivel de estudios alcanzado y el porcentaje de jóvenes que trabajan es mayor entre quienes cuentan con estudios superiores

en cambio es menor entre quienes han completado los estudios secundarios bachiller o grado medio o entre quienes solo cuentan con estudios obligatorios por tanto los indicadores en cuanto al nivel formativo también son positivos euskadi cuenta además con una tasa de abandono escolar inferior al objetivo marcado en la estrategia para europa dos mil veinte ese objetivo marcaba un diez por ciento y el indicador en euskadi se coloca en el siete por ciento

altamente cualificada además según los datos analizados las personas jóvenes en euskadi si no están trabajando están estudiando y eso favorece las oportunidades de empleo y casi nueve de cada diez personas jóvenes están o bastante satisfechos con la vida que llevan ligeramente más satisfechos que las personas mayores de veintinueve años y que las mediciones anteriores por tanto los jóvenes

que están mejor que hace unos años atrás la tasa de titulación en euskadi superior es muy elevada como le decía cercana al cincuenta por ciento y en los últimos años también ha aumentado ligeramente el conocimiento del euskera entre la juventud vasca el salario medio de la juventud ha subido en el año diecisiete

un reto importante ha aumentado el empleo encajado entre quienes trabajan seis de cada diez jóvenes como empleo tienen un empleo relacionado con su formación

la edad de emancipación de la juventud de euskadi se sitúa en un veintinueve coma seis y la tasa de emancipación entre los dieciocho y los treinta y cuatro años está en el treinta y siete coma nueve por ciento y la principal dificultad para lograr esa emancipación la emancipación de la juventud es sin duda la carestía de la vivienda teniendo que destinar

para la compra de la misma o el sesenta y nueve para el alquiler

más demandada a la hora de emanciparse y ahí desde el departamento de vivienda se están

propuestas para favorecer que los jóvenes vascos se emancipen también ha descendido el porcentaje de jóvenes en situación de sobresfuerzo económico

y solo una cuarta parte de la juventud dice ser

en lo que sí que tenemos que seguir insistiendo desde el dos mil ocho se ha duplicado el porcentaje de jóvenes con interés en la política y eso es algo positivo en el área de medio ambiente han aumentado las prácticas lideradas a la sostenibilidad y eso también es positivo

tenemos todavía muchos retos en los que debemos centrar nuestra atención y nuestros esfuerzos y gracias a la colaboración y la coordinación entre los departamentos del gobierno

que están teniendo estas medidas aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la emancipación en el ámbito de la vivienda y en el ámbito de la calidad del empleo pero los datos

una vez más usted no defrauda no me está escuchando

y voto y sería importante que prestara atención e interés también que vea los datos

y vea cómo hemos votado los jóvenes y las jóvenes de este país y cómo queda parado su partido pero es que usted es umbralismo en estado puro a hablar de mi libro nada más porque sin embargo hoy debía responder

una pregunta muy sencilla qué valoración hace usted sobre el impacto de las políticas del gobierno vasco en la juventud no qué valoración hace usted de las políticas de juventud

se lo decía en mi primera intervención solo aseguraremos un futuro para las personas jóvenes de nuestro país cuando en todas y en cada una de las decisiones políticas

el impacto de estas sobre los jóvenes y el futuro que tenemos que vivir y esto dista mucho de lo que hace en la actualidad su gobierno como usted misma lo ha dejado muy claro las políticas económicas de empleo industriales de infraestructuras o de servicios sociales también tienen un impacto sobre nosotros y eso que debe tenido en cuenta este gobierno no lo hace porque no

pero es que además el hecho de que este sistema nos dé la espalda a los jóvenes tiene otra consecuencia el alejamiento de la juventud de la política

ciudadana porque no nos sentimos representados por las políticas actuales porque es evidente que estas políticas están construyendo un mundo que no se parece en nada al que las personas jóvenes queremos vivir

sostenible solidario un mundo respetuoso con la diversidad

de dos mil once gritaba el colectivo juventud sin futuro lemas como no nos vamos nos echan

juventud sin miedo recuperando nuestro futuro esto es solo el principio decían y es que casi ocho años después el quince de marzo de dos mil dieciocho

se demuestra que lamentablemente para nosotros para las personas jóvenes esto era solo el principio y nos obligan a seguir reclamando nuestro futuro ese viernes quince de marzo del diecinueve

en ciento veinticinco países de todos los continentes ese día se volvió a demostrar que la juventud no se ve representada por las acciones llevadas a cabo por los poderes públicos y ese día la juventud de todo el mundo demostró que sí importa lo que hagamos y que nadie es demasiado pequeño como para no poder marcar la diferencia

los recortes en servicios sociales o una política económica

son aspectos centrales a la hora de que los jóvenes

porque mi generación sigue con un paro inaguantable con trabajos de mierda por doquier sin poder acceder a una vivienda digna sin poder irse quince días de vacaciones y miles de personas

a buscarse la vida y la situación es ya inaguantable porque no existe

que permita ver la luz más allá del túnel porque todas las personas tenemos un futuro que vivir aunque por desgracia quien hoy tiene que empezar su proyecto de vida con veinte años tiene un futuro mucho más incierto que quienes lo afrontamos como yo con veintinueve años mucho más incierto que quienes lo afrontan con cincuenta años y por ello señora artolazabal hace falta un proyecto de país de mirada larga que ustedes no tienen un proyecto de país que se base en que las decisiones del presente

un proyecto de país que se aleje del cortoplacismo de la tiranía electoral y de la falta de visión política en definitiva hace falta

que nos ofrezca un futuro digno a las personas jóvenes porque las políticas públicas de este gobierno nos secuestran cualquier expectativa de futuro eskerrik asko

pues yo creo en este país creo en los jóvenes de este país creo en el futuro de este país y desde luego

por las cuestiones que más les preocupan a los jóvenes de este país pero es preciso seguir mejorando y seguir trabajando

le hablo del gazte plana porque entiendo que es el plan que este gobierno ha puesto en marcha

trabajan todos los ámbitos que les preocupan a los jóvenes

ofrecerles un futuro más prometedor hemos mejorado la calidad del empleo juvenil y también estamos intentando trabajar en reducir esa precariedad laboral y que nos preocupa tanto y tenemos mucho camino por recorrer está claro pero también hemos avanzado en esta legislatura de una forma importante y para nosotros la juventud vasca es una prioridad señor

tenemos una juventud vasca similar a la más avanzada de europa y para nosotros es un orgullo nuestra juventud reduce peso en la pirámide poblacional es verdad como en todo el mundo

también está comprometida con la participación social

vascos en este momento tienen una están más preocupados por la política que lo que estaban preocupados hace unos años atrás por tanto

lo acabamos de analizar en el diagnóstico de situación de la juventud de euskadi y desde el departamento de empleo y políticas sociales desarrollamos programas como son el de garantía juvenil el de lehen aukera el de retorno juvenil el de el de la colaboración con las universidades gazte empresa emprendimiento contrato relevo formación a jóvenes de bajo cualificación el retorno a la formación para el empleo teníamos un objetivo de dar veinte mil oportunidades a los jóvenes y ya hemos dado más de dieciséis mil señor bollain

el informe aurrera begira destaca que mejora la valoración del presente por parte de nuestros jóvenes de ellos y ellas es una encuesta

han dicho que están mejor hoy en euskadi que lo que estaban hace unos años atrás también desciende su temor a tener que desplazarse de forma forzosa para trabajar a otro lugar

con los jóvenes vascos nuestra juventud considera que su familia y su salud

pero tiene lógicas dudas sobre el futuro el empleo y el dinero pero también dicen que confían más en sus capacidades y aumentan sus expectativas de emancipación y

datos objetivos señor bollain el índice de confianza en el futuro de la juventud vasca ha subido diez puntos

disponen de un mejor panorama y futuro y por tanto eso es en lo que estamos trabajando el estudio de la incorporación a la vida laboral que realiza lanbide

y por tanto esto también es un dato objetivo

están en mejor situación a la hora de encontrar un puesto de trabajo que lo que estaban hace cinco años y lo decía antes el lehendakari en dos mil trece el paro en euskadi de los jóvenes era del veintinueve por ciento y hoy esa tasa del paro está por debajo del dieciséis y es otro dato objetivo le moleste o no le moleste señor bollain otro tanto y con grandes expectativas ocurre en el área de la formación profesional y ahora

van a tener más oportunidades nuestro objetivo principal es conocer en profundidad cuáles son las expectativas a futuro y a corto plazo de nuestros jóvenes para lo que mantenemos un testaje permanente con ellos y este cuarto plan de juventud que recientemente hemos aprobado cuenta con un eje específico centrado en la emancipación y la autonomía de la juventud y esperemos que obtengamos resultados

un empleo para poder emprender una carrera profesional con los programas que ya les hemos trasladado y que están dando resultados y el acceso a la vivienda

hemos elaborado el borrador de la ley de juventud que también esperemos fije y ayude a alcanzar estos objetivos y la ley lo que pretende es fomentar las actividades facilitar la emancipación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos vascos

señora consejera la verdad es que hay temas que una parece que está empecinado en ellos porque

porque parece que no acaban de finalizarse y de resolverse yo le pregunté por esta cuestión a finales del año dos mil diecisiete y en ese momento usted señaló

esperaban ya tener ese proyecto de decreto consensuado y empezar la tramitación pero parece que sucede como

de cuajar como le decía al presentar la pregunta

y el doce de diciembre de dos mil dieciocho se aprueba la resolución

el mencionado proyecto el plazo para alegaciones finalizaba el dieciocho

según la misma información y a pesar de haber sido preguntado a su departamento en varias ocasiones no solamente por esa parlamentaria sino también por parlamentarias

cuándo entraría en vigor el mismo y en qué fecha podría estar en marcha ese registro

no se ha acabado de establecer una fecha también hemos visto recientemente la última noticia que hemos tenido que es que dentro del plan normativo del año dos mil diecinueve vuelve a aparecer este proyecto si nos puede contestar en qué medida y cómo afectaría esto a la convocatoria de subvenciones a las que en su caso podrían presentarse entidades que en este momento están trabajando

por ello simplemente señalar cómo está este asunto en este momento y por ello esperamos su respuesta eskerrik asko

en el año diecisiete finales del diecisiete por esta cuestión y le trasladé la

y que nos ha costado más tiempo del que nos hubiera gustado su trabajo articularlo de una forma definitiva la definición de este decreto la hemos estado trabajando estrechamente de la mano de las entidades que representan a la totalidad de los centros especiales de empleo en euskadi tanto los que pertenecen a ehlabe como a berezilan y también hemos trabajado con la asociación de personas con discapacidad física ese borrador ya lo tenemos y yo espero que para el próximo otoño estará aprobado la tramitación del mismo ha conllevado pues como usted hacía la relación

pública la orden del veintiocho de marzo de dos mil dieciocho hemos hecho ya las memorias técnicas justificativa y económica necesarias el veintidós de noviembre se realizó la aprobación previa del proyecto

simultáneamente para ir avanzando hemos estado recabando los informes preceptivos necesarios como son el de emakunde normalización lingüística protección de datos atención a la ciudadanía y de función pública y también me consta que el propio viceconsejero le trasladó por teléfono la situación en la que se encontraba el decreto a su vez

contar con los informes de legalidad y de control económico y yo espero que en octubre podamos llevarlo al consejo de gobierno para que se apruebe de una forma definitiva en el ámbito de las subvenciones las empresas que se registren porque el decreto

no va a tener únicamente un carácter de registro de las empresas sino que lo que pretendemos es que se definan todas las políticas activas para las personas con discapacidad y que se recojan

en este decreto que no solamente va a ser de registro sino va a ser más amplio eskerrik asko

gracias señora presidenta sí señora consejera es que

de costar porque ya existía un borrador en la anterior legislatura desde el año dos mil catorce pues llevamos con ese borrador pero es que

autónomas que lo han tenido desde hace tiempo con lo cual yo no entiendo que ya no hubiera ningún trámite en la anterior legislatura para permitir avanzar y permitir que tengamos que esperar ahora todavía hasta octubre por lo que usted

pero es que también desde la anterior legislatura venía ese objetivo que tenía su departamento de que

un marco legal más amplio un desarrollo normativo completo pero como le he dicho en otras ocasiones

no solamente hay que tenerlo sino que hay que ejercerla ejercitarla y ejercitarla bien y parece que en este aspecto

entidades que están trabajando en el sector que necesitan que ese registro de centros especiales de empleo que ese marco legal

y no lo está pues porque este decreto no acaba de ver la luz yo

si en ese decreto de alguna manera podría recogerse la retroactividad y por qué le digo lo de la retroactividad porque van a salir probablemente

este periodo de sesiones saldrán las ayudas para las entidades y claro aquellas entidades

para ellas sí que esta dilatación pues es un aspecto muy importante yo tengo que reconocer el buen funcionamiento de las entidades que ya están las que usted ha mencionado el trabajo del tercer sector en este terreno es importantísimo y lleva funcionando desde hace muchos años pero usted también es consciente de que existen otras entidades

las ayudas de este año gracias eskerrik asko

señora llanos brevemente el decreto sí lo que

recoger esos programas y esas políticas activas de empleo para personas con discapacidad el modelo de inclusión vasco es un modelo ejemplar y que desde otras

como modelo que tiene sus efectos y parte de esos buenos resultados

activa y coordinada es un decreto ambicioso lo hemos trabajado con esas entidades el tercer sector social en euskadi y en el ámbito de la discapacidad es muy importante y hemos trabajado con ellos pero también hemos trabajo con la parte de la empresa privada que también para que las personas con discapacidad tengan mayor número de oportunidades el objetivo del gobierno es conseguir la máxima inclusión para esas personas con discapacidad

desde luego sí que nos hubiese gustado haberlo traído antes pero lo que la legislatura pasada se pudo avanzar no continúa no es posible porque legalmente por lo visto no es factible y se tiene que iniciar el proceso de tramitación desde el minuto cero por tanto esperemos que ya por fin en octubre consigamos ese

beneficie tanto a las empresas de inserción social o del ámbito de la inserción social los centros especiales de empleo de iniciativa social como a esas empresas

pretenden colaborar para que las personas con discapacidad tengan mayores oportunidades mila esker eskerrik asko

bai egun on qué valoración hace de los acuerdos alcanzados en este parlamento en materia de vivienda eskerrik asko martínez jauna erantzuteko

inevitablemente es subjetiva pero sí le puedo decir que en conjunto estamos razonablemente satisfechos del grado de cumplimiento de los compromisos que hemos asumido

los hemos marcado en el plan director de vivienda dos mil dieciocho dos mil veinte

puedo afirmar que nada está afectando a los derechos y expectativas de las personas se van cumpliendo

y de capitación de vivienda privada para el alquiler social y el derecho subjetivo a la vivienda está ya extendido y aplicado

a finales de febrero teníamos ya reconocidos

y concedido cuatrocientos treinta y ocho prestaciones económicas de vivienda esta misma semana se acaban de enviar

a otros tantos hogares cuatrocientos treinta y cuatro en álava mil ochocientos once en bizkaia y seiscientos quince en gipuzkoa

podrían acceder a este derecho en el año dos mil diecinueve y por supuesto se siguen abonando las prestaciones complementarias de vivienda vinculadas a la renta de garantía se ingresos

que ha realizado usted en estos momentos y sí que le voy a relatar desde una objetividad subjetiva alguno de los incumplimientos que creo que está realizando el gobierno de los acuerdos

porque por ejemplo acordamos en julio de dos mil dieciocho un informe sobre el impacto de los pisos turísticos en el precio de alquiler ese informe tenía que estar aquí durante el año dos mil dieciocho no lo conocemos y es un informe

los pisos turísticos a los precios del alquiler sabe perfectamente que tenemos medias de mil doscientos euros por ejemplo

actuar el informe sobre medidas fiscales para incentivar el alquiler también se acordó en julio tenía que estar en enero no lo tenemos solo tenemos una evaluación de las medidas fiscales

la vivienda para tener alquiler asequible porque es un

los ayuntamientos está aprobado el quince de noviembre de dos mil dieciocho tenía que estar en el primer trimestre del dos mil diecinueve no lo tenemos

desarrollo en muchos ayuntamientos una cosa tan sencilla como un calendario lo pedí yo creo que

en este pleno tenía que estar el primer trimestre de dos mil diecinueve y no está y estamos ya a cinco sobre el decreto del derecho subjetivo a la vivienda tenía que estar ya le dimos en noviembre tiene que estar en julio pero es que usted sobre ese decreto la respuesta que me da es que para aprobar ese decreto aparte de todos los problemas administrativos necesita personal

se tienen que aclarar en ese sentido y sobre las herramientas también

vacías se podían haber hechos antes incluso de la sentencia del tribunal constitucional y ponerlas en marcha eso es lo que le pedimos desde el parlamento

se aprobase ponerlo en marcha y todavía los seguimos sin tener y utilizando el dato del gobierno tenemos veinte mil viviendas vacías para movilizar

sería un buen paliativo y lo mismo le digo estos incumplimientos estos retrasos estamos a cinco de abril muchos tenían que haber sido en el primer trimestre

no me hacen ser muy halagüeño respecto al cumplimiento y le vuelvo a decir le pedía el liderazgo y le reconoceré

que se hacen y que se hagan pero se están incumpliendo acuerdos de este parlamento en estos momentos y por eso no podemos felicitar no podemos reconocer ese trabajo

seguir haciendo lo que se seguía haciendo hasta ahora pero tenemos medidas que se tienen que poner

aquí podemos hacerlo en valencia el índice de precios está establecido y utilizan medidas fiscales para movilizar esas viviendas y para ponerlas en precio asequible en cataluña hay un registro de viviendas vacías y un impuesto a las viviendas

en el parque público sino también en el parque privado de los grandes tenedores todas estas medidas

todas estas medidas servirían para movilizar la vivienda vacía y para poner una solución al problema

eran de alquiler ese es el problema que tenemos tenemos herramientas y usémoslas señor arriola eskerrik asko martínez zatón jauna arriola jauna zurea da hitza

señor martínez ya le he reconocido de entrada que hay algún retraso pero admítame también usted

nuestro sistema de producción normativa no se caracteriza por su agilidad como usted lo sabe aunque en cambio es muy garantista y además en el ámbito de nuestro departamento muy participativo en breves fechas cerraremos y traeremos al parlamento el informe sobre la ley de vivienda avanzando tanto en la clarificación de los asuntos competenciales como en la planificación de su desarrollo reglamentario

se retomará en breve una vez respondidas las numerosas alegaciones presentadas

como ya conoce usted y lo ha citado aquí la cuestión no estriba tanto en los contenidos finales ya cerrado sino en disponer de recursos suficientes

el decreto de vivienda deshabitada ya ha iniciado su camino burocrático tras contactos previos mantenidos con eudel y es razonable suponer que verá la luz a final de este año

en el plan director de vivienda como usted sabe estamos trabajando

y también sobre incentivos fiscales seguimos intensificando las políticas de alquiler hasta el punto de que dos de cada tres viviendas en alquiler público entregadas en españa el año pasado

somos la segunda comunidad con más vivienda protegida iniciada

nuevos inicios son datos recientes del ministerio de fomento estamos trabajando en muchos frentes señor martínez por supuesto

pero sabemos a dónde queremos ir y tenemos la voluntad y algunos de los resortes necesarios para recorrer este camino que usted cree que somos lentos yo también lo creo y me gustaría que fuéramos más rápidos pero los tiempos son los que son le pido un poco de paciencia

porque le garantizo que vamos por buen camino y creo que vamos a coincidir

además de coincidir en los objetivos muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa

miren en el presupuesto para el año dos mil dieciocho

en el proyecto de presupuestos que se presentó para la uned de álava se destinaban

de las negociaciones presupuestarias nuestro grupo presentó una enmienda

a esa cantidad de tal manera que en el presupuesto de dos mil dieciocho la cantidad que aparecía era

euros las entidades

con las siguientes aportaciones en el presupuesto de dos mil dieciocho la diputación foral

el ayuntamiento de vitoria con cien mil euros la sede central de la uned

y el gobierno vasco que aunque proponía noventa y siete mil euros al final la cantidad quedó

gracias a la enmienda del grupo popular y el pasado doce de diciembre de dos mil dieciocho el gobierno aprobó la prórroga presupuestaria de ese presupuesto del dos mil dieciocho para el año dos mil diecinueve eso lo saben todos ustedes pero

dos mil dieciocho sino que además el pasado catorce de febrero la decisión plenaria del parlamento vasco aprobó la ley la ley dos

de este año que se llamaba medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio dos mil diecinueve en materia de retribuciones y otros aspectos

y el segundo punto de la disposición segunda decía en particular se entenderán prorrogadas las autorizaciones de gasto destinadas a subvenciones

en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil dieciocho siempre y cuando no financien programas o actuaciones que por su naturaleza debieron finalizar en dicho ejercicio bueno esto es absolutamente razonable si por alguna razón el gobierno

lógicamente esa cantidad no se prorroga no van a hacer un segundo puente

el pasado mes de febrero el departamento de educación comunicó

que la cantidad que les destina el gobierno vasco para el dos mil diecinueve

incumpliendo tanto la prórroga presupuestaria porque en el ejercicio en el presupuesto de dos mil ocho figuraban

tuvieran el origen que tuviera esa cantidad y también incumple la prorroga

la ley dos de dos mil diecinueve y por tanto nosotros queríamos preguntarle al gobierno la razón de que esto sucediera por qué el gobierno incumple la prórroga porque claro la cantidad que aparece es de ciento noventa y siete mil euros y por qué incumple la ley número dos

que se prorrogarán las subvenciones y además hay una cosa que nos desconcierta más y es que este criterio no se ha extendido a otras partidas de los presupuestos por ejemplo introdujimos enmiendas

que se han mantenido con la prórroga y que han cumplido la prórroga y que han cumplido la segunda ley del presente ejercicio y no solamente para la fp

por ejemplo para la universidad del país vasco nosotros introdujimos cantidades que se han mantenido entonces qué criterio tenemos

es que el gobierno no es consciente de que está vulnerando una ley y que está vulnerando una prórroga de los presupuestos

es verdaderamente incomprensible y voy a atreverme a hacer

algún juicio de intenciones es que el gobierno vasco

este me gusta y a este sí y este no me gusta y a este no porque algún criterio tendrá que haber porque ni tan siquiera la actuación con las enmiendas que presentó el grupo popular está siendo coherente

como esta de la uned de álava y es que al gobierno vasco

porque desde luego es una institución de ámbito estatal es esa la razón porque entonces habría que decirle que la uned de álava

a ciudadanos vascos ciudadanos vascos que además por múltiples razones pero entre ellas la económica la de traslados la de matrículas les resulta más económico y les resulta más ventajoso

pero no solamente eso es que las distintas universidades a distancia

otras entidades que no son universitarias como el instituto vasco de educación a distancia cada vez son más una distancia física

las nuevas tecnologías el acercamiento

o las dificultades que tenía una educación a distancia hay un acercamiento telemático hay una consulta continua hay clases

la educación a distancia como una educación efectiva que sirve a los ciudadanos vascos y que además impide cosas

incluso muchos de los materiales están también online entonces

por qué razón en este caso concreto de la uned de álava se incumple tanto

así mismo la segunda ley del presente ejercicio

dependiente del ministerio de ciencia innovación y universidades por lo que es función del ministerio garantizar la suficiencia presupuestaria para el desarrollo de sus funciones

tiene como objetivo facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para hacerlo que elijan su sistema educativo

económicas de residencia o cuales quiera otras tiene su sede central en madrid y en los campos universitarios de senda del rey y de ciudad universitaria si bien cuenta con una amplia red de centros asociados repartidos por todo el estado y fuera del estado los centros asociados sirven de apoyo a las enseñanzas de la uned en la práctica son instituciones básicas del sistema uned donde se acoge orienta y asiste presencialmente al alumno

organizan las pruebas presenciales proporcionan los recursos materiales de apoyo

son organismos autónomos que dependen de la sede central para temas académicos pero que han sido creados por iniciativa local y están patrocinados a través de los correspondientes convenios

la ley orgánica cuatro barra dos mil siete por la que se modifica la ley orgánica seis barra dos mil uno de universidades

con las universidades ubicadas en el ámbito territorial no obstante

la ley permite la formalización de convenios con las comunidades autónomas

el marco de trabajo aprobado y firmado por ambas partes y que debe ser el mecanismo de referencia y relación fundamental entre las dos instituciones es el convenio de colaboración

no se rigen por los criterios académicos del sistema universitario vasco los criterios de inserción laboral las necesidades sociales en euskadi o el euskera entre otros en definitiva

ni dependencia orgánica con el gobierno vasco ni en términos legales ni académicos tampoco en lo que se refiere a la aplicación de la política y coordinación universitaria del departamento de educación en segundo lugar siendo objetivo de ambas instituciones conseguir la mejor calidad del sistema universitario en su conjunto

con la firma del convenio se estableció la constitución de mecanismos de coordinación que permitan la articulación y vertebración de las enseñanzas universitarias presenciales y a distancia

como la formación continua y la extensión universitaria adicionalmente entre los cometidos de la comisión de coordinación figura la evaluación y seguimiento

tal y como se establece en dicho convenio el gobierno vasco a través del departamento de educación concede

idéntico tratamiento que el que reciban las correspondientes actividades de los y las estudiantes de las universidades implantadas en euskadi

para todos los centros bergara portugalete y vitoria gasteiz

una aportación basal que se corresponde con el treinta por ciento de la financiación total disponible

siendo el resto distribuido en función del volumen de alumnado matriculado en la oferta formativa en cada centro por cierto estos criterios

y refrendados en el convenio que tenemos suscrito entre ambas instituciones y son susceptibles de ser modificados siempre que la propuesta garantice un trato igual entre alumnado

deben ajustarse a las cantidades que el departamento de educación presupueste anualmente

estaban establecidas en la propuesta de presupuestos presentada en sede parlamentaria es decir se habilitaba una partida de cuatrocientos mil euros en

somos conscientes de que en los últimos años a través de enmiendas a los presupuestos de la administración general vasca se ha incrementado de forma puntual y más allá de lo previsto los recursos aportados por el departamento de educación estas aportaciones tienen consideración de extraordinarias y puntuales es decir

así pues el gobierno vasco ha mantenido su aportación estructural en este año usted cita la ley dos barra dos mil diecinueve de medidas urgentes para el ejercicio dos mil diecinueve y hacía alusión a la disposición adicional segunda me va a permitir no reproducirla

siempre y cuando no financien programas o actuaciones que por su naturaleza debieron finalizar en dicho ejercicio como ya le he dicho las aportaciones tienen consideración de extraordinarias y puntuales ya que la financiación acordada con el rectorado y en el marco del convenio

es objetivo de este gobierno seguir dando cumplimiento de manera responsable a los compromisos suscritos con la
uned eso sí en el marco del convenio de colaboración y su comisión de coordinación eskerrik asko uriarte

cuáles son los objetivos fundamentales del sistema vasco de enseñanza universitaria el euskera la igualdad la excelencia la empleabilidad la internacionalización yo no le he preguntado por eso en todo eso estamos de acuerdo sobre todo el punto de vista estamos de acuerdo

pero me ha parecido un poco extemporáneo en el marco de la interpelación que le he hecho luego cuando se ha puesto a remarcar

más de un minuto yo creo a remarcar que es que la uned no es universidad vasca

es que es universidad española claro para muchos una universidad española también es una universidad vasca pero comprendo que usted no lo comparta

el tratamiento es distinto porque es española pues no algo que es español también es vasco

el convenio de colaboración claro que sí pero si usted me dice que le parece extemporáneo lo que no entiendo es por qué ha seguido en las negociaciones de los presupuestos

cuando en realidad no estaba justificada por ninguna actividad extraordinaria usted dice que es una cantidad extraordinaria

y tal como nosotros lo planteamos lo de que es una cantidad extraordinaria pues lo dice usted ahora aquí pero en los presupuestos

euros entonces en esa partida ponía en la unidad de álava

euros no venía en dos distintas noventa y siete mil para gastos de infraestructura y cien mil para actividades no no la partida era

ahora usted nos dice que es extraordinaria yo no creo que sea extraordinaria yo creo que usted lo considera un peaje que tuvo que pagar no usted el gobierno

y que ahora dice se acabó no lo hago pero es que no puede ser señora consejera porque hay una prórroga de los presupuestos y la cantidad que aparecía era esa

se debe trasladar porque ahora usted me dice que es un gasto extraordinario

lo planteamos así en la discusión presupuestaria ni en los presupuestos que aprobamos era noventa y siete mil euros para gastos extraordinarios para actividades para

no eso no venía así usted ahora lo considera así

un peaje pero eso no es justo porque además vale será una universidad española pero atiende a ciudadanos vascos

que parece que usted lo describe como la aldea de astérix rodeado por una muralla pero sabe los que viven dentro de la aldea de astérix

no puedo lo siento mucho aceptar sus explicaciones

sobrevenidas sobrevenidas dónde está escrito en los presupuestos que euros que aparecían era para actividades de los estudiantes

yo me conozco yo me conozco y a lo mejor no lo he mirado bien pero ahí ponía ciento noventa y siete mil euros y la prueba es la sorpresa que ha tenido

cuando de repente le castigan porque se sacuden un peaje porque son una universidad española y porque usted ha decidido que de repente

era para actividades de estudiantes

no era ese en absoluto era una enmienda que hizo este grupo y lo lamento pero no puedo asumir sus explicaciones

pero se lo digo y por eso me dirijo al resto de grupos de esta cámara presentaremos esa moción para que los

aunque tienen el pecado de elegir una universidad española sean atendidos muchas gracias

que las políticas del gobierno para el dos mil diecinueve estaban establecidas en la propuesta de presupuestos presentada en sede parlamentaria posteriormente

para el ejercicio dos mil diecinueve que se ha realizado de la siguiente forma ciento noventa y dos mil trescientos treinta y cinco a uned bizkaia ciento once mil quinientos treinta y nueve a uned bergara

estas cantidades se corresponden con el número de alumnado de cada centro

la financiación pública proveniente del gobierno vasco a las universidades del sistema universitario vasco el resto de financiación es adicional por no estar así recogido en dicha ley simplemente de esta forma el gobierno vasco hace un esfuerzo superior a lo allí establecido cuando financia con recursos adicionales a otros proyectos educativos universitarios

así entendemos que el gobierno vasco atiende a la uned en euskadi y también al centro de vitoria gasteiz de forma singular esta es una cuestión que los distintos equipos rectorales de la uned han trasladado y agradecido a esta administración y en particular a este departamento

y que sí lleva a cabo el gobierno vasco me gustaría destacar asimismo que la uned es una universidad financiada por la administración general del estado

también está relacionada con nuestra aportación a través del cupo por otro lado los recursos económicos que paga el alumnado

al centro ya que un porcentaje importante de la matrícula que pagan el cuarenta por ciento

no estaría mal ya que se solicita una mayor financiación señora bengoechea que luchase también para que ese cien por ciento de lo que paga el alumnado vasco se quedará íntegramente en euskadi

opta a la beca para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores durante el curso actual ciento cuarenta y cuatro alumnos de la uned se han beneficiado de dicha beca

y no solo a través de la aportación directa a la que usted ha hecho referencia no quisiera terminar mi intervención sin dar una información adicional

se está hablando o se está solicitando un incremento de la financiación en lo que parece al centro asociado

en noviembre de dos mil dieciocho se comprobó la existencia de una sobrefinanciación

además debe usted saber que tal y como se informó en el patronato del centro asociado uned en vitoria gasteiz celebrado el pasado veinticinco de marzo en el que se aprobaron los presupuestos por unanimidad

por último quiero decirle que el centro asociado a uned en vitoria gasteiz tiene unos ingresos que ascienden a setecientos cuarenta mil euros atendiendo a mil ciento cincuenta y ocho alumnos y alumnas

euros atendiendo a tres mil ciento cuarenta y tres alumnos y alumnas y en bergara quinientos cincuenta mil doscientos veintiocho euros atendiendo a mil cuatrocientos setenta y seis alumnos y alumnas

traslación de la política universitaria que se lidera desde el departamento de educación y seguirá trabajando para que todo el alumnado vasco de la uned de euskadi reciba un trato idéntico

garantizando que los recursos económicos asignados sean razonables y se ajusten a la legalidad vigente eskerrik asko uriarte

sirviera para que quede absolutamente clara la posición del gobierno vasco en un conflicto en el que no actúa ni debe actuar como las partes implicadas directamente en el mismo esto es patronal

ante unas reivindicaciones que tienen su origen y su razón de ser en la mejora de las condiciones laborales enmarcadas en un convenio colectivo suscrito entre patronal y sindicatos

y sindicatos que ante la imposibilidad de llegar a acuerdos entre dichas partes cabe la mediación de un tercero el departamento de trabajo como ha dicho el ararteko a petición de patronal o sindicatos que el departamento de educación como garante de todo el sistema y como responsable de la educación de todo el alumnado de la comunidad autónoma está trabajando en una línea de actuación que viene

del profesorado ante la bajada de la natalidad sinceramente espero que más allá de sus diferencias sepan valorar la propuesta y sea asumida positivamente por patronales

ia kontuan hartu diren y fruto de esta falta de acuerdo reconocerán que la atención primaria se encuentra ante una situación difícil

de solucionar así las cosas el doce de abril y el diecisiete de mayo los y las profesionales de atención primaria saldrán a la calle porque consideran que la primaria

porque la plantilla está cada vez más desestabilizada las bajas o jubilaciones no se cubren y por tanto según su criterio no pueden prestar la atención asistencial que sus pacientes merecen lehen arretan etengabeko arreta guneetan edota

onartezina da estamos padeciendo listas de espera que condenan a la ciudadanía a tener que esperar más de tres cuatro y cinco y seis meses en según qué especialidades o aguardar una semana en el mejor de los casos

y es que el sistema vasco de salud es un gran puzle es un gran puzle que tiene que estar muy bien engranado porque si un eslabón se cae

por otra parte si los y las profesionales de osakidetza no están en su mejor momento no podemos decir que la situación de los y las pacientes del servicio vasco de salud sea mucho mejor

es la que sufre el aumento de listas de espera o la saturación de servicios sin ir más lejos hace poco días hemos conocido que en el hospital universitario de cruces ha habido una lista

tratamientos quimioterápicos es cierto que al día siguiente se anunció la habilitación de una sala contigua para aligerar la lista pero para nosotras esta situación vuelve una vez más a demostrar que lo que realmente ocurre es que hay una falta de planificación de servicios una falta de planificación de recursos humanos e incluso de medios materiales sailburu andrea talde honek

adierazgarriak diren hutsuneak eta gabeziak berriro ere azaltzeko y entre esas solicitudes que estas asociaciones de padres nos presentaron se plantearon cuestiones como la falta de espacios habitaciones todavía a día de hoy cuádruples con lo que eso supone

psicológica para todas las personas que pasan por este trance tanto para pacientes como familiares como para los profesionales que les atienden por cierto tiene un mandato

ese servicio en las dos unidades de oncología pediátrica ahora nos gustaría que lo cumpliese porque es que eso también forma parte del plan oncológico

va a la deriva señora consejera y a usted le toca reconducir la situación

en un plazo breve el declive lo único que va a hacer es ir agudizándose son muchos como bien hemos explicado los frentes que tiene abiertos ahora mismo plantilla a la que se le conculcan derechos plantilla envejecida y feminizada feminizada

masculinizada en ámbitos de poder plantilla que sufre día a día la brecha salarial y mientras tanto siguen sin elaborar el tan solicitado y anunciado plan de igualdad diagnóstico sí pero el plan todavía no lo hemos visto infraestructuras con falta de planificación

que no se acuerdan y que generan conflicto en definitiva

perjudicados y perjudicadas que es lo que más nos debería de preocupar beraz

cuando el pasado veinte de marzo tomé posesión de mi cargo como consejera de salud puse en valor toda la trayectoria de los treinta y seis años de historia de osakidetza porque señora blanco yo sí creo que un sistema vasco de salud osakidetza no creo

no creo que va a la deriva esta creencia no es mía la mayoría de los ciudadanos del país vasco

y en sus profesionales y creemos porque tenemos motivo para ello

es el sistema público mejor valorada por los vascos y vascas y cuenta con los mejores profesionales tal

los propios usuarios del sistema vasco de salud aunque quizás ustedes no lo compartan algo debemos haber hecho bien los

y los sucesivos gobiernos de euskadi ya que somos referentes en atención sanitaria y gozamos de la sociedad pero junto a este reconocimiento también sé que no debo caer en la autocomplacencia y todos debemos seguir trabajando y adaptándonos a las necesidades en salud de nuestros ciudadanos

no me escondo ante las situaciones adversas y asumo la responsabilidad que me corresponde y el liderazgo que usted me pide porque como en toda organización o empresa hay problemas y situaciones que mejorar pero de ahí a intentar hacer ver un declive

iruditzen comenzaré refiriéndome a las huelgas previstas para los próximos doce de abril y diecisiete de mayo en la atención primaria a la que usted ha hecho referencia

de todos los trabajadores y trabajadoras le diré que no me parece una respuesta adecuada dado que no creo que es la vía para solucionar los problemas actuales que reconozco pueda haber

y porque tampoco creo que estemos sin realizar acciones para ello tenemos en marcha un plan estratégico y un conjunto de medidas que a continuación voy a exponer para elaborar estas han surgido de meses de trabajo con diferentes personas profesionales y sectores implicados habitualmente en la atención de la ciudadanía en atención primaria estamos trabando en estrecha colaboración con los centros de salud con los con las direcciones de integración con los

con el consejo asesor de atención primaria para analizar e identificar áreas de mejora y reforzar

eta lanaren antolaketa berri bat proposatzen dugu fruto de meses de trabajo hemos presentado la estrategia de atención primaria

además de facilitar una mejor organización para los profesionales que conforman este ámbito por ejemplo nos hemos fijado como objetivo que los cupos no superen los mil cuatrocientos pacientes por médico o médica

más de un quince por ciento de pacientes mayores de setenta y cinco años para lograrlo vamos a ampliar el personal en ochenta y seis plazas

con mayor carga asistencial esta es una cuestión de primer orden en la agenda política del gobierno vasco reflejo de ello es el esfuerzo económico que implica esta medida que va a suponer una inversión

en los próximos dos años otra de las medidas que hemos puesto sobre la mesa y que estamos ya

es desburocratizar la labor del personal médico y de enfermería abrir y homogeneizar la cartera de pruebas diagnósticas que pueden solicitar

pediatras y enfermería para que sean todos ellos

también se está modificando el modelo de agenda de los propios médicos y médicas y enfermería

el número de pacientes que se visitan por día y reducir los tiempos de espera desde el departamento de salud también valoramos el papel de la enfermería merece ser potenciada para reforzar el trabajo en equipo para ello planteamos medidas como la acreditación de enfermería para la autorización y dispensación de medicamentos y productos sanitarios

meses cuando tenemos ya las herramientas para realizarlo reforzar su papel en la atención a domicilio y acciones comunitarias también se están realizando equipos para orientar su mayor eficiencia a la hora de apoyar a los equipos orientar los procesos autolimitados menos graves es un hecho como ha mencionado que hay que afrontar el reto del relevo generacional

de pediatría algo común al resto del estado y muchos países de europa en este sentido la facultad de medicina de la universidad del país vasco ha incrementado considerablemente el número de estudiantes

hemos conseguido que en euskadi se acrediten un número mayor de plazas para la formación mir en todas las especialidades pero especialmente en aquellas

y a la pediatría ofertamos el cien por ciento de las plazas acreditadas somos la única comunidad en el estado que realiza

capacidad docente el departamento de salud también está colaborando con la universidad del país vasco para impulsar la introducción de materias relacionadas

y la pediatría en atención primaria como materias y parte de los programas de estudios también

en la universidad por otro lado como he mencionado anteriormente la estrategia de atención primaria en euskadi también se marca el objetivo de mejorar la cobertura de ausencias en el marco de las condiciones laborales y las necesidades asistenciales que son cambiantes y voy a pasar a exponer alguna de estas medidas concretas tenemos un contrato flexible de un año

o no tienen estabilidad laboral puedan acceder a él en el dos mil dieciocho se contrató con esta fórmula a setenta y

y este año se prevé hacer lo mismo con más de setenta

le puedo decir que también los profesionales que voluntariamente aceptan tienen ampliación

ausencias de compañeras compañeros además se ha ampliado la edad de jubilación voluntaria a los sesenta y ocho años para quienes deseen seguir ejerciendo

rebajar la gestión de la demanda también es otro de nuestros objetivos y para ello trabajamos en potenciar el equipo y el triaje

como he mencionado también está prevista y ya tenemos medidas en marcha para

de las ochenta y seis plazas que anteriormente he hecho referencia y también para potenciar los equipos de atención primaria estamos incorporando en los circuitos de asistencia y profesionales como fisioterapeutas y estamos definiendo las funciones

respetamos el llamamiento a la huelga pero considero que con una propuesta como la que le he explicado esto puede tener una solución eskerrik asko

de la atención primaria es que tenemos un problema mucho más grave que el que usted ha admitido aquí el otro día supe que en algún centro de salud se están cubriendo bajas de atención primaria de médicos de familia de atención primaria con especialistas con cirujanos y cirujanas de ciertos hospitales esto

esto sí que demuestra una falta de planificación porque esa persona

suponemos que estará acrecentando la lista de espera en cirugía en el hospital falta de planificación le he hablado de oncología sé que luego tiene una pregunta que también contestará y será bastante más concreta pero sí que me gustaría que me dijera algo sobre lo que ha ocurrido en el hospital de cruces

quejando poniendo quejas formales durante un mes y es curioso

entonces estas cosas son las que no podemos permitir y otra vez falta de planificación que responde a la inmunoterapia que responde a tratamientos personalizados

tratamientos de inmunoterapia a todos los pacientes eso tendrá que estar planificado osakidetza señora murga es de todos y de todas de los que estamos aquí de los que estamos fuera suyo también nuestro también somos pacientes

se invierten miles de millónes de euros al año y a usted le toca gestionarlo yo le diría más a usted le toca cuidarlo vemos que cada vez hay más inversiones pero no sé muy bien dónde se materializan

se construyen los que se interesa construir porque luego también tiene una pregunta

hay comarcas abandonadas y hay comarcas hay hospitales como el hospital que ha estado años sin un euro de inversión planificación intentan elaborar planes y diagnósticos y lo invierten en ello

y este pleno este parlamento se ha ocupado muy mucho de tratar

están desaparecidos en ese ámbito están desaparecidos

muy bien valorada usted cree en osakidetza nosotras creemos

pero también creemos y estamos convencidas de que el declive como le he dicho es cada vez más evidente y le aseguro que es algo que realmente nos duele nos molesta lo que está ocurriendo

porque es evidente que no está dando sus frutos esas reuniones huelga el doce y huelga el diecisiete de mayo

ellos son los que de primera mano conocen el plan y además tienen que trabajar día a día en los centros de salud si salen a la calle por algo será por lo tanto o cambien la estrategia

es intentar llegar a un acuerdo lo que no estamos haciendo señora murga como ha dicho usted es intentando obstaculizar el trabajo de los profesionales eso no eso no porque si le parece que interpelarle a usted por los problemas que consideramos es obstaculizar el trabajo de los profesionales de osakidetza quiere decir que

y bueno voy hacer otro segundo intento espero que en el segundo turno pues me conteste a lo que realmente hemos puesto encima de la mesa confío en que tenga usted muy buena

lo que usted trae escrito para el segundo turno eskerrik asko eskerrik asko

agradezco sus explicaciones sobre el funcionamiento de la cámara estoy segura que mi memoria no va a cumplir sus expectativas lo siento

oncológica es para nosotros una absoluta prioridad usted conoce el plan oncológico que fue presentado

un plan que no ha sido reconocido parece por ustedes pero que ha sido reconocido tanto en euskadi como en las regiones y países de nuestro entorno y que busca una atención integral y mejorar la supervivencia de los pacientes hay un plan de implementación con su presupuesto y su calendario que se le presentó en el que estuve yo presente hace unos meses ondo dakizu

actualmente se diagnostican al año casi

en euskadi y la tasa de supervivencia es superior a otros países todas las organizaciones sanitarias de osakidetza con servicios de oncología desplegado ya sus comisiones de tumores y comités de tumores siguiendo las directrices establecidas en este plan para garantizar

la mejora continua de la actividad del sistema sanitario y estamos ya desplegando el plan de formación de los profesionales siguiendo el calendario que en su día presenté continuamos avanzando en la prevención y el diagnóstico precoz con el objetivo de reducir la mortalidad y mejorar la supervivencia al cáncer y no vamos a escatimar esfuerzo pero

junto al aumento de la supervivencia de los pacientes diagnosticados y tratados genera cambios

cambios que planificamos pero que requieren procesos de atención y reorganizar los espacios y cambios organizativos muestra de ello es que hablando

muchas organizaciones que participan en la atención de estos pacientes el hecho que menciona ha sido puntual el resto de hospitales con las acciones realizadas no se ha generado una situación similar

ante una situación puntual de incremento de la demanda y de pacientes en espera para el tratamiento oncológico superior a la prevista se tomaron medidas estructurales organizativas

que van a permitir o en ello estamos que no vuelva a haber una situación parecida sí es cierto el periódico donde se informan al día siguiente parecía que todo se había resuelto en menos de doce horas medidas de este tipo de incrementar consultas ordenar agendas y citar a pacientes no se realiza en menos de veinticuatro horas

que no se ha tratado de un problema de recursos humanos que ha sido es cierto necesario reorganizar el espacio físico de consulta

para habilitar las agendas en un momento determinado y que esto ha ocurrido exclusivamente en un centro de la red y que los tratamientos oncológicos de quimioterapia no se dan en centros como los que usted señala por seguridad del paciente como eibar

en este centro se ha habilitado una nueva consulta y tenemos actualmente ya lo que se considera estructuralmente necesario para dar respuesta

y podría haberse dado mejor información a los pacientes es cierto y lo reconocemos pero le quiero recordar que han sido veintiséis pacientes y de forma

otro aspecto que vamos a mejorar es la comunicación con los pacientes ante este tipo de situaciones y que creemos ha sido una de las causas que ha podido incrementar su malestar día a día se toma las medidas necesarias se planifican los servicios y se atiende

termino diciendo que trabajamos y planificamos

gracias señora presidenta señora

vimos la noticia nos pareció preocupante que una treintena de pacientes oncológicos del hospital de cruces se encontrara en situación

para recibir el tratamiento de las sesiones del tratamiento correspondiente en oncología usted ha reconocido que ha sido un error lo cual yo creo

no se repita usted ha reconocido en esta tribuna en la anterior intervención

respuesta y tengo que recordar aquí que sobre todo las quejas aparte de por el tiempo de espera han sido motivadas porque no se han recibido explicaciones

planteadas estamos hablando de pacientes oncológicos a los que se les diagnostica el cáncer

perspectiva buena en cuanto a su esperanza de vida no estamos hablando de una mera

pero a nadie se le escapa que el tratamiento de cáncer y la curación de los enfermos de cáncer con el tratamiento correspondiente puede marcar claramente la curación y las posibilidades de curación de un

y sobre todo en una lista pendiente y no obtenerse respuesta pues genera claramente un malestar evidente no solo entre los enfermos familiares

malestar también se ha generado en el propio profesional sanitario del hospital

ante esta situación sé que usted ha señalado y también tuvimos ocasión de leerlo a través de los medios de comunicación que

esta noticia pero sí entendemos señora consejera que procede una valoración suya que queríamos conseguir a través de esta pregunta

hemos entendido que ha habido una falta de diligencia en dar una respuesta adecuada a los pacientes oncológicos del hospital de cruces creo que

que se han incorporado nuevas terapias yo creo que en un ámbito en que la innovación es absolutamente relevante como es en el ámbito de los tratamientos del cáncer

en la atención que se presta a estos pacientes por eso señora consejera esperemos que situaciones de estas no se vuelvan a repetir y que aprendan un poco

los pacientes en este centro de cruces y que por lo tanto se aprenda del error cometido besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

otra vez resaltar al inicio de mi intervención la comprensión y lo que siento hacia los pacientes que se han visto afectados por las demoras y

que este tiempo de demora ha sido en un grupo puntual de pacientes que habitualmente atendemos a cientos y cientos de pacientes a los que se les ponen nuevas terapias y esto el tiempo y la diligencia ha sido

veinte días entonces quiero resaltar la diligencia de la respuesta por parte del servicio y el hospital de cruces

el tiempo de demora no ha rebasado los estándares de calidad de treinta días

hubiéramos preferido y trabajaremos para que siempre los tiempos para estas terapias sean más cortos y los tiempos y la información estén claramente y sean conocidos por los pacientes y sus familiares

se facilitó a estos pacientes inmediatamente las citas y se han hecho los cambios estructurales no en veinticuatro horas prensa realización

que es un trabajo que muy diligentemente un tiempo tomamos nota de todo lo que ocurre en la red de lo que piden nuestros pacientes y le puedo garantizar que hemos puesto las medidas

beharrezko neurriak hartu direla berriro gerta ez dadin como ya le he señalado a la señora blanco se ha habilitado una consulta médica diaria más en el hospital y una nueva consulta semanal así como el canal de comunicación

para que esto creemos que son las medidas que van a permitir se resuelva por ello

de mi responsabilidad que acabo de puntuar también quiero que se han tomado estas medidas necesarias como ustedes conocen los tiempos de espera y de necesidades son fluctuantes

y otros de menor demanda asistencial en el hospital universitario cruces y en cualquier otro hospital de la red de osakidetza la actividad está sujeta

que tiene en cuenta estas posibles fluctuaciones y cambios pero es cierto que a veces estos cambios pueden no

en la cuantía que finalmente son pero contamos inmediatamente con todos los recursos materiales y humanos disponibles para resolverlo con más razón si cabe tratándose de oncología

en las necesidades actuales y futuras hori dela eta orain arte bezala

gracias señora consejera está claro que se ha generado un perjuicio para los

pero obviamente este perjuicio no se hubiera generado si hubiera habido una planificación una previsión adecuada por osakidetza y esa sala se hubiera habilitado antes entonces solo esperar que

que ustedes hayan tomado la nota de vida y que de nada te vale tener un plan oncológico con una serie de objetivos líneas estratégicas y medidas de actuación concreta

previstas porque como ya le decía esta área específica de oncología pues se producen muchos cambios entonces las organizaciones sanitarias y los profesionales

al tanto y esa es responsabilidad de osakidetza para que no sucedan
cosas lamentables como este episodio de demorar la lista de espera a estos pacientes eskerrik asko

le pediría que fuera usted prudente a la hora de realizar frases

deja en evidencia la falta de atención adecuada para los pacientes oncológicos en cruces como señala en su pregunta hay personas en juego personas enfermas y muchos profesionales

a esta casa compañeros y compañeras parlamentarias es un asunto muy sencillo la última pregunta de la mañana solamente dos previas quería hacer esperamos que en la comisión de salud presente el plan de atención primaria que la compañera eva blanco y usted han estado comentado aquí en pleno próximamente

en el análisis de algunos problemas que se han planteado como el de oncología médica de cruces se analice también la responsabilidad en la gestión de los jefes de servicio que nunca se tocan

y en concreto cuál es la situación de los centros de salud de irala en bilbao y de zalla que tienen demoras de más de diez años en su construcción

legebiltzarkideok señor uria a nosotros también nos preocupan las inversiones en infraestructuras de atención primaria en euskadi

trescientos treinta centros de salud ambulatorios distribuidos por los tres territorios históricos en el momento actual aparte de los dos que usted señala que le preocupan le puedo decir que tenemos previstas inversiones en murgia de un millón de euros

donostia cinco millónes de euros aiete donostia cuatro millónes de euros aretxabaleta

y los dos en concreto irala bilbao dos millónes y zalla dos millónes compartimos con usted la importancia

las infraestructuras en atención primaria aunque también hago aquí el compromiso de presentar

el plan de atención primaria que usted me ha pedido en el que verá que no solo pensamos en estos dos centros de salud y en inversiones en ladrillos sino que es

inversiones en muchos otros aspectos y también cambios organizativos estas inversiones

usted menciona es cierto están realizándose y tenemos previsto que se desarrollen durante este año tanto el de irala como

en concreto le puedo decir que tenemos ya iniciados los proyectos

acciones para que se desarrollen ambos durante este año

y lo que usted ha comentado de todas formas comparta conmigo que el ladrillo no es lo más importante ekipamenduen

besten neurri asko hartu ditugu ere también vamos a invertir

en ochenta y seis nuevas plazas y en otras muchas dotaciones para los centros

eskerrik asko compañera murga es gratificante oír a veces contestaciones concretas a preguntas concretas

me preocupa que a la hora de contar por ejemplo cuántos centros de salud vienen en el ochenta y nueve en el noventa y nueve cuántos centros de salud vienen presupuestados en el

empezamos a contar y son los mismos eso es un lio porque no sabemos dónde va el dinero son así las asignaciones que usted ha dicho pero

nos ha extrañado vamos a lo concreto los casos del centro de salud de zalla acumula doce años sin inicio de las obras partidas presupuestarias asignadas y aprobadas hasta cuatro millónes usted lo ha explicado muy bien año tras año partidas que no se cumplen y el centro de salud de irala

los centros de salud de aiete en donostia alde zaharra en el mercado de la bretxa en donostia el de zuia murgia el de bilbao la vieja

han demorado un promedio de cinco años entre la decisión política y técnica y el inicio de obras

en el caso de salud de retuerto inauguración que fue el otro día

finales del dos mil nueve nueva adjudicación de proyecto en septiembre del dos mil dieciocho aún no se han iniciado las obras el centro de salud de irala en bilbao lo pactaron el ex consejero de salud rafael bengoa con el difunto ex alcalde iñaki azkuna en el dos mil once

el ayuntamiento de bilbao por fin asignó el edificio del antiguo

aún no se han iniciado las obras los centros nuevos de santutxu miribilla retuerto bilbao la vieja

de inaugurarse después de cinco y seis años de decisión de su construcción y asignación presupuestaria los centros de salud de zuia murgia aiete en donostia alde zaharra

entre cinco y seis años después de la asignación presupuestaria son necesarios cinco años

después de tomada la decisión técnica y política y haberlo consensuado con los ayuntamientos correspondientes

cómo se cuenta ese dinero es excedente qué ha pasado en el caso de irala

encarecido los centros que hemos mencionado por su demora en más de cinco años en el inicio de obra estoy hablando de más de ocho centros el veinte por ciento

como usted mismo ha señalado señor uria es cierto a veces hay proyectos que van más rápido

que tardan y en ocasiones hay aspectos como la cimentación los accesos autorizaciones arbolado y otros que han podido provocar que algunos de nuestros proyectos y obras se demoren

que trabajamos en ello y que voy a revisar con detalle los motivos que han podido hacer que hasta ahora se produzcan estas demoras para ver en la medida de lo posible porque tampoco creo que mis antecesores no tuvieran la capacidad de trabajar en ello pero intentaré hacer lo posible para que no estén

y es cierto que recientemente hemos inaugurado el de retuerto y es cierto que trabajamos en mejorar estos

remodelaciones y vamos a tener una política activa en mejorar las condiciones de los centros de salud hau baita